sabe igualmente que la ayuda nació en un contexto político determinado que no quiero calificar y que no se midieron bien los resultados quizá

residentes en aquel momento que por el cambio normativo se quedaban

a los que no habían cumplido el año y que de repente tenían que estar tres años sin cobertura económica su no transitoriedad generó distorsiones por ejemplo en los flujos no voluminosos pero sí ciertos como que bizkaia y gipuzkoa que siempre habían ido a la par en peso porcentual y sin embargo en los dos últimos años

en la tasa de inmigración segundo orígenes atípicos en localidades de poca experiencia inmigratoria previa como pueden ser ordicia el goierri y azkoitia tercero

limitadísimo y con una posible y clara tendencia a la cronificación y en consecuencia determinada bomba potencial en algunos
municipios y servicios sociales eskerrik asko toña jauna blanco andrea

que todas las modificaciones que se quieran plantear en cuanto a la rgi deben de hacerse en ese parlamento

y en qué se escuda el pnv para cargarse de un plumazo la agi dicen que lo han contrastado con el tercer sector

y no están precisamente de acuerdo con que se elimine esta ayuda lo hemos visto por las concentraciones y hoy mismo además aparece en los medios de comunicación se escudan en que no es una medida equitativa y que hay que prestar los mismos derechos en todos los territorios y estamos de acuerdo pero si quieren equidad y equiparar derechos en todos los territorios háganlo ustedes por arriba no por debajo no recortando si quieren equiparar derechos acaben con el recorte sobre la rgi impuesto en el año dos mil once

y otra de las excusas que estamos escuchando por parte del pnv para

es que esta produce un efecto llamada el número de personas extranjeras que ha llegado a gipuzkoa se ha reducido no hay efecto llamada

con unos setecientos menores a su cargo grave es la retirada de la agi pero el argumento que utilizan lo es mucho más

exactamente igual que la encuesta que han tenido que retirar de irekia gracias a nuestra denuncia igual de xenófoba y cuando el señor maroto puso en marcha su estrategiaxenófoba para poner a la ciudadanía en contra de los inmigrantes

y con los socialistas para denunciar su estrategia hoy están ustedes comportándose de la misma manera que el señor maroto están utilizando sus mismos argumentos ya nos explicarán ustedes con qué fin lo que hoy recogen los medios de comunicación sobre cáritas

toda herramienta que refuerce o ayude al desarrollo del sistema de protección social lo valoramos como algo positivo por el contrario todo lo que suponga establecer límites restricciones o supresiones lo consideramos como algo negativo eh bildu suscribe esas afirmaciones y lo comparte usted señor consejero comparte esas afirmaciones creo que eso sí me puede contestar lo que no se puede hacer señor toña

contándole a los medios de comunicación a los refugiados y luego dar la espalda a estas personas

ekarri además señora blanco la agi no desaparece se sigue manteniendo para personas y familias

en casos como los de la protección social no deberíamos promover gabinetes de ocurrencias señora blanco miremos a la luna y no al dedo fortalezcamos las bases sociales que legitiman las protecciones sociales hasta donde podemos con los límites presupuestarios que tenemos esto es la luna que se haya mencionado el término efecto llamada como usted ha hecho

crear problemas donde no los hay es una forma de despistarse ante los problemas reales

zurea da hitza gracias presidenta buenos días señor lehendakari

el pasado otoño su portavoz confirmó los fallos en las previsiones de recaudación de dos mil quince que iban a obligar a acomodar el gasto lo que todos entendimos como

la secretaria general de los socialistas vascos idoia mendia le urgió a una reunión

para abordar estrategias de futuro y para exprimir nuestras posibilidades de autogobierno

un día después de esa petición su consejero de hacienda matizó lo expuesto por su portavoz diciendo que el pinchazo en la recaudación de bizkaia apenas supondría alguna inejecución del uno coma cinco por ciento de los presupuestos algo que calificó como habitual

a no reducir los recursos en aquellas políticas que los socialistas considerábamos esenciales educación sanidad políticas sociales apoyo al empleo y a la actividad económica en la liquidación provisional del año pasado las inejecuciones presupuestarias suponen el seis coma trece por ciento del presupuesto cuatro veces más de lo que ustedes consideraban habitual

y principalmente en las áreas implicadas en el apoyo al empleo y a la actividad nadie de su gobierno ha dado una mínima explicación política a pesar de que llevan semanas
en plena vorágine mediática y por eso se las pedimos aquí en esta cámara que le dio un mandato en el año dos mil quince y que ha incumplido eskerrik asko

los créditos comprometidos del presupuesto han alcanzado el noventa y seis por ciento y las obligaciones reconocidas a treinta y uno de diciembre han superado el noventa y cuatro por ciento si exceptuamos los créditos presupuestarios para la construcción del tren de alta velocidad la realización presupuestaria alcanza

y esta información señora corcuera es pública y con estas cifras no se puede hablar de una

como usted hace lo que sí se puede destacar es que el gobierno está preservando los programas correspondientes al modelo vasco de protección social que es nuestra prioridad para intentar no dejar a nadie atrás así la ejecución del departamento de empleo y políticas sociales ha alcanzado el noventa y nueve por ciento

más del noventa y ocho por ciento y salud prácticamente el cien por ciento todos los programas los servicios y las ayudas prácticamente al cien por ciento por lo tanto en cuanto a recortes cero recortes en los servicios públicos esenciales de euskadi en cuanto al departamento de desarrollo económico y competitividad

la explicación es que se ha procedido a la redefinición de la red vasca de ciencia tecnología e innovación y también a una reordenación

lo que ha llevado que algunos hayan sido culminados antes del treinta y uno de diciembre otros no aunque sí se han incorporado en dos mil dieciséis todo ello ha sido además comunicado a los agentes interesados las distintas líneas de subvención previstas en promoción de la investigación innovación internacionalización se han puesto en marcha y se están realizando la ejecución de la política de reactivación económica y empleo

gracias presidenta lamento decirle lehendakari que ha faltado a su palabra

en políticas y materias prioritarias para el futuro de la sociedad vasca han recortado seiscientos sesenta y dos millónes de euros doscientos nueve han sido para subvenciones que no se han otorgado y no han invertido en capital productivo cuatrocientos cuarenta y cuatro millónes de euros no han gestionado bien porque se puede cumplir con las obligaciones presupuestarias y priorizar gastos sin poner en entredicho el futuro de euskadi pero ustedes dejan de gastar ciento treinta millónes de euros en desarrollo económico y competitividad no han recortado en sanidad o educación o en rgi porque no han podido porque son derechos subjetivos no han recortado en inversiones en proyectos que se diseñaron la legislatura pasada

aunque lo intentaron por la presión de esta cámara pero han dejado de invertir lehendakari trece millónes de euros en programas industriales

y no valen excusas lehendakari el gobierno socialista en lo peor de la crisis puso a euskadi a la cabeza europea en investigación e innovación y su gabinete ha perdido posiciones no ejecutan no priorizan y además es que gastan mal porque mantienen programas

las principales fuentes de creación de trabajo y de empleo en euskadi y dejan de invertir trece millónes de euros

no han ejecutado el programa del contrato relevo para los jóvenes no han ejecutado los planes de formación para parados de larga duración que provienen de la construcción

gastos en materias que suponen duplicidades con otras administraciones e incluso solapamientos

a los focos a los micrófonos han huido de ellos y de esta cámara para no dar explicaciones el pasado otoño lehendakari ocultaron la verdad y faltaron a su palabra

mostrando las tijeras con estos recortes del dos mil quince señor lehendakari han demostrado que no tienen respuesta para los desafíos del futuro de euskadi y lo que nos tememos peor
es que podemos perder el futuro eskerrik asko corcuera andrea lehendakari jauna zurea da hitza

quiere que le recuerde la capacidad de déficit a la que recurrió el gobierno lópez

este gobierno quiere que le recuerde la multiplicación por diez de la deuda pública del gobierno vasco por parte del gobierno lópez quiere que le recuerde también los mensajes de patxi lópez

como gobierno vasco en la prestación de servicios esenciales públicos mire rigor recortes

ha sido de un cero coma sesenta y nueve y el límite era del cero coma siete

hemos completado la capacidad de gasto cumpliendo además el límite de déficit también de endeudamiento y la regla de gasto déficit además impuesto por ustedes con el partido popular en una reforma exprés de la constitución española de cara a dos mil dieciséis se está planteando una flexibilización

mire siempre lo hemos defendido y creemos que es necesario para avanzar en las políticas precisamente de estímulo a la economía productiva y en cualquier caso estamos pendientes de esta decisión

la solidaridad y la garantía de los servicios esenciales a la ciudadanía

cuando este gobierno está aplicando todos los programas a empresas autónomos profesionales emprendedores

y según lo que dicen los indicadores hoy mismo hoy mismo en los medios de comunicación de lo que es la evolución de la economía vasca y de lo que es la evolución de la empresa vasca señora

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari

prácticamente desde que usted tomó posesión y su gobierno nos han estado dando el mantra

que es un invento de estos palabros nacionalistas que dan a entender algo que habrá que entender como que sufrimos un recorte de competencias más o menos

cuando dos administraciones tienen problemas o criterios o piensan distinto para eso están los tribunales para resolver esos conflictos de competencias

nosotros cuando hicimos la pregunta la verdad que se nos ha quedado un poco obsoleta porque la pregunta era si

que este mantra que nos estaban dando y ya la solución ya la hemos visto

y con el tema verdad de en fin añorar el antiguo régimen pero el antiguo régimen del siglo no del diecinueve sino del dieciocho

una real cancillería de valladolid que resolvía también estas cuestiones en cualquier caso con los datos que el gobierno nos ha facilitado

doscientos cuarenta y cuatro leyes el gobierno vasco con los datos que nos ha dado solo ha planteado veintitrés conflictos de los cuales más de la mitad se ha llegado a acuerdo en la comisión bilateral entre los dos gobiernos es decir no se ha acudido no se ha acudido al recurso al tribunal constitucional el tribunal constitucional además

con lo cual parece que se desmonta hasta todo lo que se nos ha estado vendiendo de que es que los tribunales

parece que eso no es así o no ha sido así incluso en fin con el grupo con el que más veces se ha llegado a acuerdos

ha sido con el gobierno vasco incluida la ley del concierto que nos da nuevas competencias por lo tanto yo no sé si la excusa para pedir un nuevo estatus político es esta pero parece como argumento cuando menos pelín vergonzoso y por eso le reiteramos nuestra pregunta de verdad se cree el lehendakari

señor damborenea ha utilizado dos términos invento y mantra

invento mire la aprobación de la lomce

su intento de imposición es un invento la utilización intensiva del real decreto ley un instrumento que limita la intervención de las comunidades autónomas es un invento señor damborenea creo que es significativo

y sus derivadas en leyes del gobierno español

situamos la denuncia de la recentralización en el incumplimiento del estatuto de gernika según el tercero de los documentos entregados a la ponencia de autogobierno

el hecho de que el gobierno vasco haya ha tenido que interponer recurso de inconstitucionalidad en veintitrés ocasiones que usted ha reconocido es un invento

se cuestiona la cuantía y alcance de las becas del sistema educativo vasco

y personal de sanidad se han iniciado conflictos contra leyes aprobadas por este parlamento dopaje en el deporte cajas de ahorros prestaciones sanitarias vivienda fracking la pretensión de recentralización por parte del gobierno español señor damborenea no es un invento

una actitud permanente que responde a una estrategia deliberada del gobierno español durante toda la legislatura y que no denunciamos solamente el gobierno vasco también gobiernos de otras comunidades incluso gobiernos en manos del partido popular

en el informe entregado al parlamento vasco una degradación práctica de la capacidad del autogobierno que supone socavar el bienestar y oportunidades a la ciudadanía

señor lehendakari estrategia la suya la lomce acuerdo de la comisión bilateral entre los dos gobiernos pero el gobierno vasco tenía que mantener el recurso esta foto es de este mes

de educación en el ministerio de educación negociando cuarenta millónes de euros para la implantación de la formación profesional básica

y para recibir cuarenta millónes de euros esto es de este mes y esto es un acuerdo de su gobierno sobre la lomce con el gobierno de españa

como ha hecho el gobierno vasco para que se suprima la palabra españa de las tarjetas que ponen sistema nacional de salud de españa

mire bastantes problemas tenemos en esta comunidad para que se inventen nuevos seguimos teniendo los mismos cuando usted llegó al gobierno el mismo paro

los jóvenes se siguen yendo y tenemos unas perspectivas

además es el mismo paro ahora que el de hace tres años sí usted se lo cree

ha habido acuerdos sí claro que ha habido acuerdos en la mayoría de los casos parciales y ha habido acuerdos como consecuencia de que había una pretensión de invasión de competencias y hemos recurrido a la comisión bilateral claro pero

por qué veintitrés recursos ha habido acuerdos causados por decisiones que afectan gravemente a nuestro autogobierno acuerdos enmarcados en la capacidad competencial de euskadi

sí y los desacuerdos ahora bien los informes que el gobierno vasco remitió a este parlamento el día quince de septiembre documentan

aportan las pruebas de unas políticas recentralizadoras de carácter estructural de intensidad desconocida hasta el momento y esto es lo que décimos desde el gobierno vasco

insisto situamos también la recentralización en el incumplimiento del estatuto de gernika pasando los años como van pasando

cuasi constitucional de nuestro autogobierno y se constata una actitud renuente del estado a mantener una relación bilateral y pactada esa

derivaría por ejemplo de la actualización de ese concepto de pase foral

recurrir a un mantra es recurrir a los derechos históricos

no se acepta un sistema efectivo de garantías para el autogobierno vasco y esto es lo que denunciamos y esto es lo que reivindicamos garantía de cumplimiento del autogobierno vasco actualizado

señoras y señores consejeros señor lehendakari recientemente como consecuencia del escándalo de los papeles de panamá de empleo apuntaba acertadamente que cualquier persona física o jurídica que utilice alguna estrategia de ingeniería fiscal para defraudar nos está robando a todos nosotros y efectivamente nosotros estamos de acuerdo con esta afirmación

quien defrauda nos roba a todos quien elude o evade impuestos nos roba a todos quien mantiene dinero en paraísos fiscales nos roba a todos

estos comportamientos hay que denunciarlos contundentemente y usted señor lehendakari también tiene que denunciar alguno de estos comportamientos porque hay muchas

recientemente un juzgado de san sebastián ha admitido a trámite una querella presentada contra varios altos cargos de la diputación foral de gipuzkoa empezando por su diputado general del partido nacionalista vasco por los presuntos delitos de

a la real sociedad la condonación fue admitida por la propia real sociedad después de que lo detectara el tribunal vasco de cuentas públicas y el anterior director de hacienda de la diputación foral de gipuzkoa pagar en b es defraudar eludir impuestos es defraudar dinero en paraísos fiscales es defraudar es robar a los ciudadanos pero yo le hago otra pregunta que está evidentemente relacionada con estas cuestiones en su opinión
condonar deudas tributarias a un equipo de fútbol es robar a los ciudadanos gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

sí gracias presidenta señor consejero me está tomando el pelo en relación a la pregunta que le he hecho ni siquiera usted sino al señor lehendakari

si condonar deudas tributarias a un equipo de fútbol es robar a los ciudadanos o no y nosotros pensamos que sí de eso en concreto estamos hablando y efectivamente es lo que al parecer se ha producido y los responsables son determinados dirigentes de su propio partido político señor esta es la realidad de los hechos dejar prescribir treinta millónes de euros de iva y cuatro de sanciones de iva

en la diputación foral de gipuzkoa por eso hay una querella y por eso ha sido admitida a trámite se condonó una deuda tributaria

ni del plan conjunto ni cosa parecida estamos hablando de que unos dirigentes del partido nacionalista vasco supuestamente y parece que se va a demostrar en breve

en su momento condonaron deudas tributarias a un equipo de fútbol por seis coma cuatro millónes de euros además de dejar prescribir millónes

y esto hay que denunciarlo está bien evidentemente denunciar a determinados dirigentes por los papeles de panamá evidentemente

pero hay que denunciar también estos comportamientos que dirigentes de su propio partido político han llevado a cabo en los últimos años y es lo que queremos denunciar

cuando hay más fraude evidentemente el gobierno vasco tiene menos dinero y por lo tanto hay menos estado del bienestar y los perjudicados son los ciudadanos la pregunta es clara y se la repito señor lehendakari usted considera que condonar deudas tributarias

nosotros pensamos que sí pero salga usted y usted por favor contesta conteste porque es una pregunta muy importante gracias eskerrik asko maneiro jauna

hau esan zuen que era una injerencia absoluta

vasco y nosotros creemos que en este caso no hay que mirar a madrid no hay que intentar poner el foco en madrid y en una injerencia contra el autogobierno vasco hay que mirar

de euskadi porque la amenaza del fracking en la comunidad autónoma vasca

enara y angosto les voy a recordar la pregunta que hizo el grupo euskal herria bildu al poco de aprobarse la ley por esta cámara y le preguntábamos al gobierno vasco en concreto a la consejería de industria y política energética si el departamento

y la respuesta fue conocer los recursos energéticos y minerales propios es un deber y una responsabilidad no delegables del gobierno vasco en particular y de cualquier gobierno en general

y de garantía de suministro por lo tanto le preguntamos si iban a seguir con los planes de fractura hidráulica y nos decían que sí en base a que creen que es necesario dicen conocer los recursos

lo que tengo claro es que un deber de un gobierno debe de ser cumplir lo que un parlamento le dice y en este caso un parlamento

y ciudadanas que trajeron una propuesta de ley a ese parlamento eso debería de ser el primer deber y en este caso y con el fracking ustedes hacen pase foral esa herramienta que esta semana ha sacado el lehendakari del baúl de los recuerdos el pase foral pero en este caso no hacen pase foral a una norma emanada de las cortes de castilla como se hacía antiguamente hacen pase foral a una norma emanada del parlamento de tres territorios históricos de araba y gipuzkoa es un nuevo mecanismo de pase foral el que ustedes ponen en marcha con el tema de la fractura hidráulica le están haciendo pase foral mientras siguen con los permisos de fractura hidráulica con una ley aprobado en este parlamento con un mandato muy claro por la ciudadanía de que se olviden

ustedes siguiendo con esos permisos le están haciendo pase foral

sí gracias presidenta buenos días lehendakari consejeros

el tema el mismo que el anterior redactado de otra manera pero la preocupación es la misma

soy la segunda parlamentaria que plantea este tema en este mismo pleno

las explicaciones del señor erkoreka para intentar completar mi intervención incluso para intentar a ver si usted se moja un poco más

no quiero ponerlo en duda yo me leo las respuestas que nos manda normalmente la señora tapia respecto a este tema y en la última concretamente

de modo escrito nos planteaba todo lo que usted le ha explicado al señor maeztu en la primera intervención

en la cámara vasca pero es verdad que usted habla de este gobierno

faltaría más pero los grupos parlamentarios que conseguimos llevar a cabo la ilp que se trajo al parlamento también queremos actuar dentro de la ley porque conocíamos qué había pasado con leyes que se habían aprobado en otras comunidades autónomas y siempre nos planteamos que no podíamos aprobar una ley que fuera titular de un día

el fracking campara a sus anchas en el país vasco

y por eso trabajamos mucho en los aspectos jurídicos del tema trabajamos con la ley catalana y sabíamos cuáles eran los flecos que tenía esa ley

incluso tuvimos la suerte de poder hablar con alguien del ministerio del gobierno del señor rajoy

esta ilp fuera legal por tanto creo que lo hicimos todo trabajamos las leyes

pudimos trabajar con abogados incluso con gente que trabajaba

la ley sale con todos los impedimentos del pnv todos y cada uno de los impedimentos que desde el gobierno y desde el partido del gobierno se pusieron en las ruedas y se intentó que se aprobara una moratoria que nosotros entendíamos que no terminaba de solucionar el tema y hoy estamos ante una situación que nosotros nos planteábamos desde el principio entendíamos que desde luego el gobierno del señor rajoy iba a intentar recurrir la ley

porque aunque es verdad que los argumentos son jurídicos el debate también es ideológico entonces yo en eso comparto con el señor maeztu no todo es jurídico en el tema del fracking

pero es ideológico porque los partidos políticos tenemos diferente ideología en la manera de llevar la energía a cabo ser nuclear o antinuclear también es ideológico

y el tema del fracking también el partido popular tiene una forma de entender la energía que ellos la defienden y que nosotros no la compartimos

que esto también forma parte de la ideología política y ahí la preocupación que nos viene con este recurso partiendo de que entendemos que el partido nacionalista vasco quiere en el gobierno quiere que todo sea legal que quiere llevar a cabo esta ley desde la legalidad a las respuestas me remito la pregunta que tenemos es si esta ley

por el tribunal constitucional el gobierno vasco va a defender la voluntad de esta cámara o va a seguir intentando que el fracking sea desarrollado en euskadi

sabemos que la ley fue aprobada aquí y que madrid ha llevado el recurso al constitucional y ahora

puede defenderla o no cumplirla desde luego porque es de obligado cumplimiento pero si la ley no existe el gobierno vasco

porque eso es lo que nos preocupa porque una vez aprobada la ley ustedes siguieron queriendo meter dinero en el presupuesto de la comunidad autónoma para seguir desarrollando el fracking

aunque no es una proposición de ley ni no de ley es por favor aunque el tribunal constitucional tumbe esta ley mantengan la voluntad que ha dicho esta cámara y que de facto aunque no haya falta una norma el gobierno lleve a cabo

eso es la preocupación de esta interpelación y de la interpelación anterior ya sabemos hasta dónde pueden ir nuestras herramientas jurídicas hoy y luego algo que a mí me parece fuerte que el señor erkoreka no ha hecho ningún comentario

es aquello que dijo la señora lópez de ocariz de que efectivamente el gobierno vasco

para que efectivamente esta ley fuera declarada inconstitucional quiero creer que no

del partido nacionalista vasco y nadie del gobierno salió a desmentir esas afirmaciones y entenderá que en un tema

el grupo que no lo apoyaba pues la preocupación está ahí y entonces

en cómo fue en qué se prohíben en qué no se prohíbe qué va a hacer el gobierno del señor urkullu si esta ley finalmente por el tribunal constitucional va a seguir intentando explorar e investigar y seguir dando dinero a una empresa pública de las arcas

que cuando llega este recurso es la primera que sale y dice vulneración de las competencias

podemos trabajar nosotros porque efectivamente la ley vasca habla de agua de medio ambiente y de suelo y eso es competencia de la comunidad autónoma

a que en el tema del fracking todo quede en palabras y usted señor erkoreka al final de la última intervención del señor maeztu ha dicho igual dentro de un mes estamos in ley

la política del gobierno en el tema del fracking qué quiere decir con condicionará

seguirán poniendo dinero público para investigar si efectivamente hay gas o no gas intentarán explorar intentarán explotar porque eso es lo que le preocupa a los ciudadanos vascos que estaban radicalmente contra el fracking eso es qué condicionará claro que hoy tenemos que igual mañana no la tenemos pero el gobierno vasco tendrá que posicionarse políticamente sobre qué tipo de energía quiere llevar a cabo en qué quiere invertir el dinero público en un momento en el que efectivamente las arcas públicas están como están y qué es lo que pretende hacer

para seguir haciendo lo que siempre han querido hacer porque yo creo que el problema con el fracking es que este gobierno nunca habló claro decía una cosa y la contraria

y todavía tenemos que oír a algunos representantes públicos hace poco hace unas semanas en un debate

porque ha luchado contra el fracking cuando todos sabemos que efectivamente eso no es así entonces

me gustaría aclarar la parte más política qué pretende hacer el pnv si el tribunal constitucional acaba suspendiendo la ley que esta cámara aprobó que venía de una iniciativa legislativa popular

y que desde luego intentamos unir todos los flecos para que jurídicamente fuera legal eso es lo que nos gustaría hacer el partido nacionalista vasco va a seguir metiendo dinero público para desarrollar algo que no quieren los ciudadanos vascos porque esto como lo hablábamos ayer como se ha hablado

también es autogobierno también forma parte de la herramienta de la que nos hemos dotado para ver qué tipo de políticas queremos hacer dentro de nuestras competencias y a mi intervención espero no recibir únicamente respuestas jurídicas que ya me las sé he estado seis años trabajando la ley del fracking me sé la ley de la rioja la ley catalana

entonces yo quiero saber la parte política van a defender la voluntad de euskadi respecto al fracking

de lo que hace madrid para acabar haciendo lo que a ustedes les parece sin olvidar

que ha pretendido explotar el fracking con dinero público íntegramente en el que no hay una empresa privada que arriesgue un duro por tanto

y repito una vez aprobada esta ley ustedes metieron partidas presupuestarias para que esto siguiera adelante y si no es por el acuerdo con el partido socialista

por tanto qué es lo que pretenden hacer con este tema eskerrik asko rojo andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

celebren dos interpelaciones sucesivas otorga

intervienen en segundo lugar en la medida en que hay una cierta parte del debate no irrelevante creo yo sino sustancial

esto nos permite a todos ahorrarnos algunas consideraciones algunas reflexiones que ya las

concretando más el campo del debate yo creo que he hecho un reconocimiento explícito del buen trabajo jurídico que hizo la cámara cuando afrontó la regulación de este aspecto me llamó la atención la sutileza con la que en el propio

de treinta de junio se hablaba de las condiciones adicionales de protección medioambiental las leyes recurridas y declaradas inconstitucionales por el tribunal constitucional

de la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica creo recordar que la propia iniciativa que se registró en la cámara aquí se expresaba en idénticos términos estábamos hablando de una prohibición absoluta e incondicionada que a esas alturas ya empezaba a saberse que

por el tribunal constitucional por tanto he reconocido efectivamente la calidad técnica del trabajo que se desarrolló en esta misma cámara

admito que efectivamente este es un debate que tiene múltiples dimensiones tiene una dimensión ideológica innegable tiene una dimensión económica

y tiene una dimensión jurídica que yo creo que en estos momentos es prioritaria en el sentido

la cuestión relativa a la fractura hidráulica está regulada a través de un sistema complejo que a partir del año dos mil trece

y que además en lo que respecta a esta comunidad autónoma a partir del momento que se interpone el recurso por parte del gobierno central pero todavía no sabemos exactamente cuál es su alcance y contenido no sabemos una cosa decisiva

el que la ley acabe dentro de una semana suspendida en su totalidad o parcialmente o no lo esté usted me dice pero esto es irrelevante pero cómo me dice usted esto sí esto no es irrelevante desde el punto de vista jurídico porque

poderes públicos en el ámbito de la comunidad autónoma vamos a tener que desarrollar nuestra actividad

en primer lugar de lo que establezca esta ley de lo que establezca la ley aprobada por la cámara y en segundo lugar del texto del resto del ordenamiento jurídico entonces usted a partir de ahí me dice no el debate es ideológico bien pero también tiene un aspecto prioritariamente jurídico que no podemos soslayar mañana mismo o el año que viene mismo podemos encontrarnos con un marco jurídico completamente distinto y eso no es irrelevante no es precisamente indiferente también en su interpelación las consideraciones jurídicas por lo menos en el texto escrito son importantes y yo en fin tiene que ser necesariamente así no podemos el factor jurídico en este debate usted me dice pero si finalmente la ley se declara inconstitucional

en fin el gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que en la sentencia que finalmente dicte el tribunal constitucional en esta materia

la ley aprobada por la cámara se esté o no de acuerdo con su contenido quien esté comprometido con la competencia de la comunidad autónoma debe afirmar la posibilidad que tienen sus instituciones las instituciones de la comunidad autónoma

por tanto yo espero que esa sentencia no se produzca y cuando he hecho algún llamamiento a la cautela en la formulación de expresiones en la

porque hay declaraciones hay debates que pueden facilitar la defensa jurídica ante el tribunal constitucional de la ley aprobada por la cámara y hay también declaraciones que lo pueden dificultar y le aseguro que el seguimiento que hace la abogacía del estado de las actuaciones oficiales de las instituciones vascas a la hora de determinar alcance y contenido de las leyes es importante por tanto permítame en primer lugar que me resista a situarme en la hipótesis

la de que el tribunal constitucional declare contrario a la constitución la ley aprobada por la cámara de medidas adicionales de protección medioambiental

nadie respondió a las insinuaciones de la señora lópez de ocariz yo recuerdo una pregunta que se formuló al gobierno en relación precisamente con esas declaraciones que respondí yo justamente además en las fechas en las que se reunía la comisión bilateral de cooperación aquí desde esta misma tribuna

oficial y válida por tanto que el gobierno vasco había tenido con el gobierno central para abordar esa cuestión se celebraba en aquellos días esto se produjo en torno al doce de noviembre del año dos mil quince yo mismo lo dije y dije que en absoluto

que en la representación oficial del gobierno vasco en la comisión bilateral de cooperación

de la competencia del parlamento de las instituciones autónomas para aprobar esa ley

se articuló a través de esa vía y en esa vía le puedo asegurar que ni yo que no estuve personalmente pero ninguno de los colaboradores que forman parte

ninguna ley autonómica en absoluto esto lo puedo negar absolutamente en lo que se refiere a los cauces oficiales de comunicación pero ya lo dije no diga usted que nadie se pronunció en esta línea porque en esta misma cámara en esta misma tribuna lo dije en aquella fecha bien

cabe la posibilidad de que se suspenda la ley por parte del tribunal constitucional total o parcialmente cabe la posibilidad esto no se puede negar pero

otro planteamiento va a ser no solamente aprobar los mandatos de este parlamento traducidos en norma jurídica sino también todo tipo de resoluciones todo

por supuesto que sí pero no es irrelevante lo que vaya a ocurrir con la ley

del recurso porque en este momento es que no sabemos exactamente ni cuáles son los preceptos que quiere impugnar ni cuáles son las alegaciones y los argumentos que quiere utilizar el gobierno central para impugnar la disposición ni tan siquiera insisto si se va a invocar

y no es irrelevante en cualquier caso la voluntad del gobierno es la de seguir respetando el marco jurídico en esta materia

una legalidad que viene marcada en primer lugar por esta ley por la ley seis barra dos mil quince de treinta de junio y en segundo lugar por el resto del ordenamiento jurídico porque esta ley como le decía el señor maeztu no cuelga de las nubes

dentro del cual se tiene que interpretar y aplicar esto es así como cualquier jurista lo sabe por tanto la actitud del gobierno va a ser

a una voluntad que parece emerger en el congreso de los diputados alternativa al régimen actual ya se ha aprobado una resolución por parte de la comisión de industria que ha sido apoyada entre otros también por el grupo parlamentario

una resolución que apunta ya un cambio legislativo en esta materia

pero esta mayoría alternativa ya emerge ya toma cuerpo y ya empieza a fijar posiciones entonces

esta materia cuando en primer lugar no sabemos exactamente qué va a suponer el recurso ya interpuesto por el gobierno en relación con la ley aprobada por esta cámara

en un panorama parlamentario en el que las mayorías han cambiado y la voluntad ya explícita es la de promover una modificación de esa normativa básica

y en segundo lugar por supuesto de las resoluciones que puedan aprobarse también en el parlamento vasco para orientar para impulsar

presidenta mire señor erkoreka es que siguen huyendo del tema usted me ha dado vueltas y vueltas y estoy de acuerdo podemos esperar y además debemos esperar a ver qué pasa efectivamente con ese recurso

que estos humildes parlamentarios estén en el ojo de los abogados del estado pues muy bien a ver si les podemos ayudar un poco más a entender el tema del fracking en euskadi me parece bien

esta cámara hiciera una ley que

de los vascos tan defendido por el partido nacionalista vasco en unos momentos más que en otros todo hay que decirlo

hiciera un recurso de inconstitucionalidad porque entendería que euskadi no puede decidir sobre el derecho a decidir

seguirían defendiéndolo porque forma parte del ideario del pnv y dirían

de una ley aprobado por los vascos con el derecho a decidir usted tendría clara la posición política del gobierno vasco

ante una ley como la ley que intenta prohibir no genéricamente porque ya sabíamos lo que hacíamos con la ley intenta que el fracking no sea una técnica desarrollada en euskadi

usted sabe qué es lo que opina el gobierno vasco otra cosa es que políticamente no le convenga decirlo pero es que es así porque si no me parecería que el partido nacionalista vasco no tiene posición política respecto a la extracción de hidrocarburos y como sé que la tiene y todos la conocemos

si efectivamente el tribunal la suspende pues el gobierno vasco es defensor de continuar con la investigación y la exploración porque nos parece muy responsable que si hay gas debajo de la tierra pueda ser un futuro económico para euskadi

es que es lógico porque forma parte de lo que ustedes entienden que es el fracking pero díganlo no me diga que

tumbe la ley es que hay que poner porque como en todo y usted que sabe de política mucho más que yo además de por edad porque sabe siempre suele haber plan a y plan b

además normalmente funciona tener dos posibilidades y usted sabe cuál es la situación si se tumba la ley

lo que pasa que ustedes no quieren decir efectivamente que van a continuar con esto y menos a las puertas de una campaña electoral cuando en la anterior campaña electoral una de las banderas era

entonces no nos mientan a mí me parece mucho mejor que el partido político diga lo que opina me parece mucho más lógico luego otra cosa le voy a decir

la señora lópez de ocariz que no está en este momento no dijo en ningún momento que esa petición de inconstitucionalidad de la ley había sido en la reunión bilateral

porque hombre me parecería un poco fuerte que lo dijera ahí lo que dijo es que desde el gobierno vasco llegan voces que dicen que esa ley es inconstitucional eso es lo que dice

es que no es lo mismo no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho por último le diré

que aunque la ley sea suspendida el gobierno del señor urkullu

es que me da hasta la risa pero si no cumplen la mayoría de las proposiciones no de ley en la que ustedes no forman parte de la votación le puedo poner ejemplos de áreas que llevo yo montes de vitoria

es que les da igual es que ustedes no cumplen lo que dijo este parlamento pero como ese tema hay muchos en cada una de las áreas

y en lo que ustedes participan y han formado parte del acuerdo en lo que no y en lo que no les interesa competencia de madrid entonces no me diga

el día reclamando que este gobierno cumpla lo que esta cámara manda y le pondré otro ejemplo pobreza energética resolución número cuarenta y dos del pleno de siete de noviembre

pero que me está contando si yo sé lo que va a pasar lo que pasa que me gustaría que usted lo dijera

y acaba suspendiéndola el partido nacionalista vasco volverá con lo que estaba lo disfrazarán le llamarán de otra manera y si está cerca de las elecciones igual lo dejan parado pero díganlo digan que ustedes entienden que es justo explorar la tierra para ver si hay gas pero dejen de marear hablen claro qué es lo que van a hacer
igual que harían con el derecho a decidir es lo único que les pido eskerrik asko rojo andrea erkoreka jauna zurea da hitza

señora rojo he extraído de su última intervención dos conclusiones primero que no le gusta el derecho a decidir

y segundo que no solamente insiste en la idea de que el debate sobre el fracking es eminentemente ideológico y político sino que en este ámbito parece ser que se constatan modulaciones de las diferentes formaciones políticas entorno a la posición que mantienen a propósito

modulaciones que yo que soy jurista nunca me he movido en el mundo de la energía la primera idea que tuve del fracking fue cuando vi en televisión a patxi lópez defendiendo el fracking ardientemente con un casco puesto creo que estaba en los estados unidos yo entonces no formaba parte de la política vasca en stricto

de exploración de explotación de recursos hidráulicos o de recursos

fue a través precisamente del partido socialista y de la venta que ustedes hicieron del asunto pues efectivamente ahí no puedo estar más de acuerdo con usted efectivamente hay modulaciones

a propósito de las posiciones políticas yo creo que hay un dato al que he hecho referencia yo en mi intervención en las dos intervenciones que creo que es

importantísimo del que ha resultado una resolución que cuenta con un aval mayoritario de la cámara y que apunta probablemente a un cambio importante de la norma básica de la normativa básica que va a disciplinar esta materia

regularizar las cámaras y actuar con normalidad en la producción legislativa

y casualidad ciudadanos que creo que había suscrito con ustedes un acuerdo que se ha abstenido

no quiero decir que las modulaciones políticas aquí pues sí a veces se producen maridajes con quien no es tan contundente en lo que a uno le parece que es esencial para fijar posiciones en relación con determinadas políticas por tanto discrepo de usted en lo del derecho a decidir yo sí soy partidario del derecho a decidir y coincido con usted

por evoluciones de las formaciones políticas según las circunstancias del momento tiempo y del lugar a partir de ahí

hace a propósito del cumplimiento de las resoluciones de la cámara por parte del gobierno cada semestre cosa que no ha ocurrido jamás hasta ahora hasta esta legislatura cada semestre el gobierno remite a la cámara y se presenta en la cámara formar por un alto cargo un informe que da cuenta

efectivamente hay resoluciones que se han cumplido en mayor grado otras en menor grado

no puedo compartir con usted esa evaluación que hace esa absolutamente negativa ese balance rotundamente negativo del nivel de cumplimiento

hay muchas resoluciones que están cumplidas en todo o en parte y hay muchas resoluciones en las que ha habido voluntad de ejecución por parte del ejecutivo pero no todas las resoluciones resultan materializables siempre porque la cámara tiene sus condicionantes a la hora de alcanzar sus consensos y no siempre

de propuestas o de resoluciones que son ejecutables en cualquier caso yo no puedo más que

el gobierno se moverá siempre en el estricto marco de la legalidad tomando como primera referencia la ley aprobada por esta cámara como primera referencia pero no solo como la ley aprobada en esta cámara porque es la primera pero no es la única

en el marco del cual se tiene que interpretar y se tiene que aplicar y por supuesto las resoluciones que haya en esta cámara en la materia

una relación civilizada entre el parlamento y el ejecutivo en un régimen parlamentario como es el actual eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos buenos días lehendakari consejeros usted señor lehendakari hace unos días en la presentación de sus mil días de gobierno sacaba pecho

sobre la aplicación de su programa de gobierno y hoy mismo nos ha dicho aquí que euskadi

las comunidades que más progreso más desarrollo más evolución han tenido pues bien coincidirá conmigo en que uno de los principales indicadores de progreso de desarrollo

es necesario apostar de forma decidida por el transporte público y por el transporte sostenible pero eso no puede quedarse en un eslogan ni en una promesa incumplida

un eslogan el compromiso por la sostenibilidad para ello es necesario ofrecer alternativas reales de un uso de medios de transporte no contaminantes que además

el metro representa una apuesta estratégica por un transporte limpio seguro y sostenible cuya importancia creo que no la pone en duda nadie el metro ha supuesto

un elemento de cohesión social y de cohesión ciudadana además de un elemento importante de dinamización económica

muy amplias y en españa ciudades como madrid y barcelona no dejan de ampliar sus líneas y desde luego a ritmos muchísimo más rápidos de lo que lo hacemos aquí

eso que tanto les gusta a ustedes y ofrecer una red de transporte que se vaya acercando a los parámetros de las principales ciudades europeas de las principales ciudades del resto de españa la ampliación de líneas se hace imprescindible

que esté en continua expansión y que garantice la conectividad para que esa vertebración del territorio para que esa conectividad sea una realidad es necesario que esa red no se detenga que esa red no se pare que se complete con nuevas conexiones y con nuevos puntos de encuentro y que llegue am más puntos de bilbao y de bizkaia y dentro de esa red es necesario por las líneas cuatro y cinco del metro que son fundamentales la una conectaría los barrios bilbaínos de matiko y rekalde y la cinco llegaría hasta galdakao es más hasta el barrio de usansolo con un área de influencia importante

y usted y su partido así lo entendían han sido proyectos comprometidos y prometidos a la ciudadanía

señor lehendakari con el que usted se presentó a esas elecciones hace cuatro años así lo recogía recogía como uno de los compromisos el desarrollo del sistema ferroviario urbano metropolitano

y sé que lo recogía porque lo he visto esta misma semana porque dado el devenir de las líneas ya

pues bien unas líneas cuya historia pasa por distintas vicisitudes dependiendo de si se está en la oposición o si se está en el gobierno todavía recuerdo señor lehendakari cuando yo era concejala en el ayuntamiento de galdakao y en el gobierno vasco no estaba el partido nacionalista vasco una de las primeras reuniones

porque en ese momento se criticaba el retraso de la línea cinco de metro y se exigía así se exigía desde el ayuntamiento de galdakao que se incluyesen fondos en los presupuestos del dos mil doce para ese línea

el de la puesta en marcha de esta infraestructura también ese año dos mil dieciséis exigieron que fuera la puesta en marcha de la línea cuatro pero señor lehendakari a pesar de llevarlo en el programa electoral usted en el año dos mil catorce

siguientes no tiene previsto impulsar las líneas cuatro y cinco del metro

que señala que en esta legislatura es decir la que irá hasta el dos mil diecinueve la línea cuatro tendrá que esperar y la línea cinco también lo último que hemos sabido

supedita la construcción de estas líneas a la evolución de la recaudación

que espera conocer la recaudación para que de acuerdo con el gobierno vasco con su gobierno señor urkullu se establezcan los plazos y las prioridades

apasionadamente hace cinco años ahora tienen que esperar a ver cuánto se recauda para establecer los plazos y las prioridades yo le pregunto esa expresión del desarrollo de las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao contenido en su programa electoral qué significa

lo mismo que para el resto de los mortales creemos que una inversión tan importante requiere compromiso requiere seriedad y requiere rigor y todo eso ha faltado en estos años esta estructura debiera de ser una apuesta conjunta no ha sido más que un objeto de pelea y con tratamiento y exigencia distintas dependiendo de si se estuviese en el gobierno o si se estaba en la oposición ahora parece que hay mas acuerdo

entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi parece que hay más acuerdo sí pero más acuerdo para seguir dilatando en el tiempo una infraestructura tan importante

que los vecinos de galdakao tengan que seguir en la lanzadera parece claro señor lehendakari que los proyectos de construcción de las líneas cuatro y cinco del metro son un buen recurso electoral una promesa recurrente del partido nacionalista vasco pero que en la práctica en la práctica son muy poco compromiso político y presupuestario por parte de los que gobiernan la verdad es que no ha habido ni un solo candidato del partido nacionalista vasco que no haya tirado de estos proyectos en campaña electoral

pero a estas alturas ya sabemos que los vecinos de bilbao de rekalde de matiko los vecinos de galdakao van a tener que esperar sentados para disfrutar

eso es gestión señor lehendakari eso es balance de gestión estas son en otras ocasiones en las que ustedes tienen que rendir cuenta de lo que han prometido y lo que en realidad ha hecho que dista mucho mucho

esas explicaciones a la ciudadanía porque parece que lo que vale para ustedes sin embargo no vale para otros en numerosas ocasiones han cargado contra la administración central por no cumplir sus compromisos en algunas infraestructuras vascas tenemos bien presente las críticas que ustedes hacen al trazado de la

es una cuestión en una cuestión además en las que ustedes saben que

muchas trabas pero ustedes ya le digo no han tenido reparo en cargar contra madrid contra la falta de compromiso económico y político incluso en un contexto económico mucho más difícil que el propio con muchas más estrecheces presupuestarias

no lo consideran utilizan ya le digo no dos varas de medir como yo suelo decir dos sistemas métricos diferentes el que vale para ustedes y en el que vale para los demás y ahora nos encontramos con que las líneas cuatro y cinco del metro

cuando usted se presentó a las elecciones y que tendremos que esperar al nuevo programa electoral en las siguientes elecciones para darle un nuevo empujón pero claro con empujones electorales las líneas

nos encontramos en esa en que desde el partido nacionalista vasco y desde el gobierno vasco se les llena la boca para criticar a madrid pero que sin embargo no dicen nada cuando tienen que dar cuenta de sus propias responsabilidades y compromisos la verdad es que repasando lo hecho en bilbao en los últimos años la transformación urbanística

hay una gran implicación del gobierno central la verdad algo a lo que todavía se resienten a reconocer los dirigentes nacionalistas uno ve el acuerdo lo importante que es lo que para la mayoría ha sido uno de los mejores ejemplos de cooperación institucional entre gobierno central gobierno vasco diputación de bizkaia y ayuntamiento de bilbao para algunos no es una buena fórmula y el tiempo está demostrando que esa cooperación ese compromiso institucional diverso es el que ha permitido avanzar en bilbao esa nueva dirección y ese compromiso es el que debiera hacer que las líneas cuatro y cinco fuera una realidad ese compromiso debiera existir para impulsarlas no para retrasarlas

con otras formaciones políticas con otras instituciones pero para seguir retrasando

yo le pregunto cuáles han sido las razones de este

realmente es un compromiso para este gobierno o lo va a volver a sacar en campaña

si egun on guztioi berriro ere señora llanos para ver hacia dónde vamos

a todas las cuestiones de movilidad no está de más recordar

todo lo recorrido porque nos ayuda a poner en valor el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos efectivamente el metro de bilbao es un ejemplo de movilidad de cohesión de vertebración de un territorio de elemento tractor de un entorno urbano y eso lo sabemos pero no porque lo sepamos

para el gran bilbao ha sido una gran revolución tiene veinte años su desarrollo ha sido posible gracias a los convenios de colaboración y financiación entre gobierno vasco y diputación foral de bizkaia fundamentalmente

empezando siempre por la preparación de estudios y proyectos la construcción y explotación de las líneas uno y dos se articuló a través del consorcio de transportes de bizkaia donde están representados el gobierno vasco y la diputación foral y los ayuntamientos de la zona y la financiación tanto en la construcción

y la diputación foral de bizkaia quiero recordarle en este punto que la deuda todavía

en el caso de la línea tres la financiación de las obras en curso se está realizando directamente por el gobierno vasco y la diputación foral de bizkaia al cincuenta por ciento a través

en este caso estamos hablando de una inversión de doscientos setenta y nueve millónes de euros

y por eso están en curso los estudios y los proyectos de las líneas cuatro y cinco a la que usted se refiere

la línea cuatro es una prolongación de la línea tres la longitud total de la actuación supera cinco kilómetros y contará con seis nuevas estaciones conectará en la estación de matiko y tras dar servicio a la zona de pio décimo en deusto

en moyua se realiza un nuevo intercambiador con las líneas uno y dos para evitar la saturación que en caso contrario se produce en casco viejo tiene una estación en rekalde cuyo vestíbulo

en esta estación terminará la línea y asociada a la misma estará el mango de maniobras ubicado inmediatamente después de la estación y aprovechando la alineación de la calle altube

a una profundidad de unos cuarenta metros situado en planta entre la calle irala y la avenida kirikiño en su intersección con la avenida bergara y con la travesía irala la estación será de las de esquema clásico en caverna con dos mezaninas de acceso a los andenes uno de los cañones de salida tendrá salida

el cañón de salida de la mezanina norte se ubica en un tramo de la calle monasterio que será necesario peatonalizar un ascensor se situará en la mezanina norte y en el exterior emerge la esquina entre las calles irala y avenida bergara para su ubicación se propone el ensanchamiento de acera

alguna plaza de aparcamiento la estación de zabalburu se encuentra a una profundidad aproximada de veinticinco metros

uno de los cañones de salida termina en la calle general concha y con este cañón se conecta al ascensor que aparece en la superficie

es la más compleja y emblemática de la actuación constituye el punto de conexión de las líneas uno dos y la nueva línea cuatro y se plantea como una única estación de intercambio en lugar de dos estaciones interconectadas la propuesta apuesta por mantener las cualidades y características del metro claridad de circulaciones rotundidad formas y materiales

como las estaciones de sarriko y ansio así una vez que el viajero accede a la estación de moyua tiene una visión global del conjunto y del recorrido

también tenemos otra estación en parque con una configuración similar a las que le he explicado

en deusto universidad que se encuentra bajo la confluencia de la avenida lehendakari aguirre con la calle ramón y cajal en la zona cercana a la plaza pio décimo y a unos treinta metros

dos del metro la longitud total supera seis kilómetros y cuenta con cinco estaciones

donde se ubicará un nuevo intercambiador con el ferrocarril proveniente de gernika y durango para a continuación cruzar bajo el río nervión y dar servicio al casco urbano de galdácano en una primera fase y al hospital comarcal de galdácano en fase posterior

por lo que se prevé una vía de conexión para facilitar su mantenimiento la estación tiene cuatro vías cuatro andenes permite el intercambio de viajeros entre las líneas ferroviarias

estación de aperribai que es una estación muy sencilla con un andén central construida a cielo

en un espacio muy complicado otra estación en bengoetxe

tanto como al polígono industrial ubicado inmediatamente al sur de la carretera nacional seiscientos treinta y cuatro

otra estación en galdácano la estación de galdácano se implanta en el núcleo urbano de galdácano en el entorno de la plaza roja

a la misma tiene una longitud de ciento ocho metros engloba andenes vías vestíbulos distribución con tres accesos al exterior estación también en el hospital la estación del hospital se implanta en las inmediaciones del hospital comarcal de galdácano está condicionada su posición con respecto a este por las propias instalaciones del hospital y los servicios que allí se prestan así como por la presencia del edificio de aparcamientos de este equipamiento sanitario

la nacional doscientos cuarenta esta nacional a una cota muy por debajo del hospital que está ubicado en un alto como usted sabe la caverna se ubica en planta entre esta carretera y el edificio de aparcamientos anexo al hospital de galdácano la considerable diferencia de cota

mediante la implantación de ascensores la caverna de la estación además necesitará dos salidas de emergencia

en el punto que estamos en la redacción de estudios concreción definición de trazados etcétera que estamos tanto con la línea cuatro como con la línea cinco es un resumen a groso modo de las futuras líneas y por supuesto desde nuestra parte si desean profundizar

mucho más técnica de lo que son estas líneas

y en eso estamos trabajando para poner una movilidad integrada

con la implantación de la interoperabilidad en los transportes implantación del billete único que como usted sabe continúa dando pasos importantes y le animo a que para continuar en esta transformación urbanística de bilbao también pongan el mismo empeño en llevar a cabo

el soterramiento de las vías del tren en abando y la transformación urbanística

de toda la actuación urbanística necesaria a través de los medios del ministerio de fomento y con la colaboración del gobierno vasco que como usted sabe

seguir trabajando en la transformación de bilbao en la transformación urbanística de bilbao

como con las transformaciones urbanísticas como con la regeneración de la ría y la limpieza de la ría y también en los retos que nos abordan al futuro línea cuatro

entrada del tren de alta velocidad en bilbao eskerrik asko eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta la verdad es que y mira que en esta cámara

pero créame que menos mal que la tengo porque sino yo pedía le interpelaba a usted señor lehendakari

que también es una cuestión política es una cuestión de dar cuenta del resultado de la gestión en un punto concreto usted que tanto le gusta hablar de las personas realmente el transporte sí que es muy importante para las personas y desde muchos aspectos lo que pasa es que claro hay que pasar del eslogan hay que pasar del programa hay que pasar del papel a los hechos

y decía lo de mi capacidad de sorpresa porque de verdad

la contestación que usted nos ha dado aquí nos remite el proyecto e igual

que si uno pone y va a wikipedia que creo que los vecinos de bilbao y los de galdakao

cuando vayan a wikipedia porque en el resto unos van a seguir

que el metro llegue a su barrio y los otros montados en la lanzadera ahora ya sin problemas de que los baje la ertzaintza

por peleas de patio de colegios entre dos partidos pero en la lanzadera yo no sé y ya

lo del soterramiento es que aprovechan cualquier ocasión de verdad

absolutamente lastimosos de que en este caso no le pueden echar la culpa a madrid

encantados encantadísimos de decir es que madrid no nos deja hacer las obras del metro

estarían encantados claro es una lástima que aquí esto es gestión propia

propia de cuál es la prioridad de este gobierno y tenemos que esperar a ver la recaudación presupuestaria según las últimas para ver

desde el momento de las elecciones que venía en su programa electoral pero no ahora hay que ver cómo va la recaudación para establecer los plazos que yo no sé si nos lo contará en la siguiente porque en la anterior nada de nada

ahora a ver cuánto se recauda ahora eso sí eso sí para otras administraciones da igual que tuvieran el déficit que tuvieran da igual que tuvieran las estrecheces presupuestarias que tenían todo eso da igual si eso no se realiza se hacen recortes

ustedes no hacen recortes ustedes hacen ajustes

ya les digo lo de la utilización del lenguaje lázaro carreter es su

para buscar sinónimos a las distintas cuestiones no hablamos de caída de audiencia sino de evolución de las audiencias no hablamos de recortes sino ajustes y a ver yo estoy esperando

en esta infraestructura a ver cuál es el sinónimo que usted me pone a ver cuál es el sinónimo que usted me pone porque ya le digo es que lo demandaban apasionadamente

en el ayuntamiento de galdakao exigían al gobierno vasco si hicieron una manifestación promovida por ustedes para que tenía que estar el metro en usánsolo y vamos al año siguiente ya tenía que haber compromiso presupuestario y tenía que estar en el dos mil dieciséis y estamos en el dos mil dieciséis y no tenemos ni tan siquiera plazos todavía vamos a estudiar cuáles son los plazos y las prioridades para construir esto

esto es su gestión y no me extraña que usted hoy no haya querido salir aquí porque la verdad para dar la contestación de la señora oregi si la da usted en ella es inexplicable pero en usted

porque si esa es la explicación de cuáles son los propósitos que tiene

explicarles un proyecto técnico yo les invito a que eso lo expliquen en campaña electoral que expliquen lo que tienen

promesas porque ustedes prometen en campaña electoral obras por todas las esquinas eso sí cuando luego hay que establecer las prioridades

señora llanos siento decirle que eso no era una explicación técnica

muy sucinta y reitero que si quiere conocer con todo detalle los proyectos porque en ello estamos está invitada a verlos con nosotros

de mil amores en el momento actual en relación con el metro de bilbao estamos en plena cuenta atrás para poner en marcha la línea tres y ahí hemos centrado los esfuerzos económicos principales del gobierno vasco y de la diputación foral de bizkaia en la finalización

total insisto de doscientos setenta y nueve millónes de euros con un esfuerzo financiero importante para ambas instituciones no nos hemos olvidado de la línea uno y dos hemos realizado y están en curso diversas actuaciones en la línea uno por ejemplo

lo mismo ocurre también con la línea dos que sigue su marcha y sigue requiriendo también inversiones hemos puesto en servicio por ejemplo el tramo de santurtzi cabieces

por otra parte la inversión en la línea tres asciende a doscientos setenta y nueve millónes de euros

estamos poniendo la línea tres a punto estamos mirando al futuro pero vamos mirando

vertebran el territorio y generan transformación urbanística eso nos requiere una mirada

y una mirada con calma y sosiego sin olvidarnos de seguir trabajando en las demás líneas le recuerdo que somos estrictos cumplidores del déficit y que además

respetamos y preservamos los servicios sociales en primer lugar este gobierno es responsable y no se va a meter en más cosas de las que se pueden financiar o pagar eso significa que vamos a parar que vamos a dejar de hacer obras significa que vamos a ser responsables con el gasto responsables con las inversiones en movilidad y que por supuesto vamos a atender a las necesidades y al equilibrio territorial

uno y dos también de la línea tres también del metro de donostialdea también de la ampliación del tranvía también de la eliminación de pasos a nivel la lista es larga es muy amplia respecto al tema de la pregunta y por concretar más le diré que estamos desarrollando como ha quedado patente los estudios y proyectos necesarios para la futura construcción de la línea cinco

y la línea cuatro matiko moyua rekalde la situación de los proyectos es en línea cinco estamos pendientes de aprobar

están finalizados y este mes de mayo licitaremos los proyectos de instalaciones y equipos

y se están estudiando las ofertas recibidas para su adjudicación el desarrollo de las líneas cuatro y cinco efectivamente

y de la capacidad para realizar y consensuar esfuerzos como no puede ser de otro modo sobra decir pero lo digo por si acaso que el gobierno vasco sigue manteniendo su apuesta por el desarrollo de metro bilbao

sino por el conjunto de la transformación de la ciudad de bilbao y que la línea tres supone un punto y seguido y que las inversiones deben a continuar sobra decirlo pero lo digo porque aunque está demás no quisiera que nadie lo echara de menos nuestro compromiso es muy firme eskerrik asko

presidenta señor lehendakari preguntábamos si el gobierno había planteado a donostia san sebastián capital europea de la cultura alguna

folletos informativos de una de sus acciones la calificación de la banda

y cultural en concreto en el folleto informativo elaborado por los responsables de la capitalidad donostiarra para la presentación de la exposición mil novecientos ochenta y nueve tras las conversaciones de argel delirio y tregua que se podrá contemplar

del once de agosto el gobierno vasco forma parte del patronato y aporta importantes cantidades económicas para la capitalidad europea ese lenguaje hace

es un insulto definir así a una banda terrorista el propio alcalde de san sebastián del partido nacionalista vasco anunció que era partidario de

inequívoco de considerar a eta como un fenómeno terrorista

que calificó de error este hecho y anunció que se va a subsanar es importante que se subsane

este miércoles pasado y respalda la calificación de eta como fenómeno

por lo tanto no nos queda más remedio que mantener la pregunta y exigir a la consejera en primer lugar que nos diga si respalda a su viceconsejero y al propio lehendakari

se tome la decisión contundente de cambiar todos los folletos y planteamientos relacionados con esa exposición porque no podemos permitir

que provoca dolor en las víctimas del terrorismo y en todos aquellos que fueron perseguidos extorsionados y asesinados por la banda terrorista eta no podemos permitir

de expresiones por lo tanto el gobierno tiene que actuar tiene que decir que no está de acuerdo con esa expresión tiene que decir que efectivamente eta no fue un fenómeno cultural

la inmediata e inequívoca en fin decisión de corregir esa expresión no se puede calificar a eta como un fenómeno cultural por lo tanto la pregunta es clara ha mostrado su gobierno alguna alegación a que donostia san sebastián califique a eta como un fenómeno político
y cultural va a plantear alguna alegación gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sí señor maneiro el gobierno se ha interesado por esta cuestión y ha obtenido además una explicación una respuesta

tratado de paz es un proyecto de la capitalidad europea de la cultura y una de sus propuestas es la exposición titulada tras las conversaciones de argel

en el que aparece la expresión que usted cita se califica la actividad de eta como terrorista en el mismo leído en su conjunto de ninguna de las maneras cabe deducir

ningún sentido enaltecedor de eta es evidente que sacada de contexto la expresión es muy desafortunada usted ha citado las palabras del alcalde y tanto el propio alcalde como también las palabras de la directora de derechos humanos que lo es del gobierno vasco

del patronato de la fundación donostia dos mil dieciséis

planteó corregir el texto quiso dejar claro además el compromiso de la capitalidad y de todas las instituciones que forman parte de la fundación en el rechazo al terrorismo de eta

lo ratificó con el respaldo de todas las instituciones y hoy lo reitero como lehendakari y en nombre del gobierno vasco reitero además lo que

consejera de educación política lingüística y cultura declaró este mismo miércoles en el patronato a todas las instituciones que integramos la capitalidad una posición inequívoca de rechazo a lo que ha sido eta para este país palabras públicas de la consejera en representación de todo el departamento y de todo el gobierno

es el núcleo central de todo el proyecto de la capitalidad europea de la cultura dos mil dieciséis esta es también la idea principal que vertebra toda su programación incluida

reiteró que eta es un fenómeno cultural va

a su viceconsejero que esto no puede decirse ni admitirse va a pedir su dimisión en caso de que no pida disculpas en todo caso yo le quiero responder con algunas palabras escritas recientemente por el señor aramburu llueve sobre mojado

que es congruente con las políticas desarrolladas desde el gobierno vasco la afirmación de que eta es un fenómeno cultural resulta ofensiva

a la ignorancia o a la mala fe denominar a eta fenómeno cultural solo es posible desde la banalización de lo que la cultura significa la cultura es vida

ambas fueron despreciadas y negadas por eta por lo tanto señor lehendakari tiene que decir estas cosas de manera clara y tiene que explicárselo también

en todo caso le pregunto si va a pedir a su viceconsejero que dimita o que pida disculpas eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

referencia a las palabras exactas del viceconsejero en todo caso yo ya no sé cómo responderle a usted la verdad a preguntas que en relación a esta cuestión suele formular no sé cómo responderle porque le he citado lo que ha sido la rectificación por parte de la capitalidad

le he citado las palabras de la directora de derechos humanos que usted mismo había citado previamente que lo es del gobierno vasco la directora de derechos humanos y convivencia

le he citado las palabras de la señora consejera que lo es del gobierno vasco le he citado también la descontextualización a la que usted llega con las palabras del viceconsejero mire insisto y reitero que la corrección de la capitalidad se produjo de forma inmediata sin dar lugar a ningún género de duda

en el patronato diciendo a todas las instituciones que integramos la capitalidad nos une una posición inequívoca de rechazo a lo que ha sido eta para este país palabras públicas de la consejera en representación de todo el departamento y de todo el gobierno se lo he dicho en la primera intervención

porque esta es una cuestión muy relevante y me corresponde dejar muy claro ante la sociedad vasca que primero

al igual que todas las instituciones vascas frente al terrorismo y la violencia es e incuestionable segundo el núcleo central de la capitalidad cultural es la convivencia su lema así lo expresa convivir es vivir con y tercero el objetivo de la exposición tratado de paz es la paz y el derecho

su pretensión de que esta realidad parezca lo contrario de lo que es no tiene sentido

señor lehendakari la ley de publicidad establece muy claramente para qué son

y para qué no pueden ser tienen que ser para informar a la ciudadanía de nuevos servicios derechos obligaciones valores

pero está expresamente prohibido en el artículo cinco destinar dinero público a hacer campañas que tenga como finalidad destacar los logros de gestión

es decir el autobombo desde hace un mes más o menos se pueden escuchar en las emisoras de radio de euskadi cuñas publicitarias contratadas por el departamento de salud

manifiesta literalmente lo siguiente me preparo a conciencia para que confíen en mi cuando se trata de la salud es imprescindible observar preguntar atender también cuido ayudo y sirvo lo doy todo

el que llevamos en el corazón nuestro equipo y el mensaje se cierra con el consabido gobierno vasco compromiso con las personas y la pregunta es muy directa

o consejo sanitario se pretende trasladar a la ciudadanía con esta campaña eskerrik asko pastor jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

las personas son el eje central de la acción del gobierno vasco y del departamento de salud la salud y el sistema sanitario constituyen

que viven en euskadi en la manera que influyen de manera determinante en calidad de vida y el bienestar

el sistema sanitario de todos es además una herramienta de cohesión de la sociedad vasca y por lo tanto un factor clave de nuestro modelo social al cual dedicamos una parte muyimportante del presupuesto del gobierno

es uno de los servicios públicos mejor valorados y con mayor prestigio entre la sociedad vasca un servicio de salud impulsado a lo largo de sus treinta y tres años por los distintos ejecutivos autonómicos

es contar con profesionales competentes y comprometidos como los y las trabajadores de nuestro sistema sanitario

y el apoyo de las instituciones vascas y el reconocimiento de la sociedad a la que prestan sus servicios y que no siempre sienten osakidetza

en el gobierno vasco al igual que en la sociedad vasca nos sentimos orgullosos del trabajo del personal

está en buenas manos y que el esfuerzo de los y las profesionales debe ser reconocido hori izan da zabaldu nahi izan dugun mezua euskal gizartearen

este gobierno tiene un problema serio con la publicidad o una fijación varios cargos del ejecutivo están ahora mismo imputados en los tribunales por asunto de compra de informaciones a medios afines y en esta cámara se le ha reprochado reiteradamente la arbitrariedad con que se utilizan estos recursos pero ustedes siguen erre que erre

y mi grupo no va a criticar que difundan como están haciendo también el alquiler de viviendas vacías o que la gente recurra a kontsumobide o el programa lehen aukera

otras cosas con el dinero de todos que quiera ocultar con publicidad su gestión o más exactamente su falta de gestión hoy mismo se ha recordado aquí que este gobierno dejó de gastar en dos mil quince un total de seiscientos sesenta y uno millónes de euros

sin embargo en publicidad hay que reconocerles que ustedes gastan con toda la eficacia del mundo incluso para no vender nada solo una imagen y apariencia y como no me ha respondido a la pregunta

usted no me ha dicho si se difunde algún servicio alguna prestación algún consejo sanitario como mucho

que no parecen estar por cierto precisamente muy contentos con su gestión en lo que hace referencia a la salud

la publicidad institucional que está pagada con dinero de todos no es precisamente ni para hacer relaciones públicas ni para mejorar la imagen del consejero de turno no es así permítame que se lo diga como se demuestra ese compromiso con las personas con el que nos aburren

coincidirá conmigo en que si empieza usted su segundo turno diciendo que yo no le respondido exactamente a la pregunta

la relación que tiene con una campaña en relación con la confianza

la sanidad es un trabajo en equipo y la confianza que diariamente

sobre todo del trabajo y del esfuerzo que realizan sus profesionales las personas que ha visto usted en la campaña o las que ha oído que está en marcha desde el pasado once de abril son profesionales de osakidetza

voluntariamente profesionales que han querido tomar parte en la campaña

el trabajo en equipo y valores esos que usted ha mencionado también en la primera intervención quisiera también volver a aprovechar esta intervención para agradecer

el trabajo que a diario realizan en todos los centros

el reconocimiento de la sociedad vasca que confía en ellos y ellas y agradece su implicación esa conflictividad que usted me recordaba

y vamos bastante a los centros igual es que a usted le gustaría que hubiera más que la que realmente hay es más de una ocasión a lo largo de esta legislatura se nos ha acusado

ha pasado ya mucho tiempo desde el inicio el tiempo y el trabajo realizado han demostrado que nada más lejos de nuestra intención

hemos querido poner en valor el sistema sanitario público y sobre todo a sus profesionales eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamaikagarren gaia

gracias presidenta señor lehendakari señora consejera el pasado catorce de marzo

blas de otero el dieciocho de abril se recibió la respuesta de escasas cinco líneas en la que

vasco ni ha previsto ni piensa realizar ningún acto para conmemorar la efeméride citada en nuestra opinión un grave error yo le pregunto señora consejera cuáles son los motivos del gobierno para no realizar ni apoyar ningún acto de homenaje en el centenario del nacimiento del poeta

cuatro poemas ángel fieramente humano en castellano o pido la paz y la palabra son

conservar y salvaguardar dicha obra como parte importante y valiosísima de nuestro patrimonio cultural y este gobierno como le digo muy consciente de la importantica y riqueza de su obra

pero lo que ha hecho no lo ha hecho solo este año que efectivamente coincide con el centenario de su nacimiento sino que lo ha previsto anualmente

en cuanto a las celebraciones del centenario este gobierno cree en la sociedad civil y nos parece que la iniciativa de las posibles celebraciones corresponden a la fundación

sí gracias presidenta sí efectivamente creemos que el gobierno vasco ha olvidado al poeta

escrita y pensamos que ha olvidado al poeta

porque no plantea ningún homenaje o celebración de su centenario y por lo tanto a partir de ahí pensamos que efectivamente este gobierno no hace absolutamente nada para recordar quién fue este poeta tan extraordinario y tan importante usted

de su centenario cabe exigirle al gobierno vasco algo más es decir que impulse

concreta para recordar a este poeta y es efectivamente lo que nosotros pedimos a través de esta pregunta el quince de marzo de mil novecientos dieciséis nació

durante los años treinta formó parte de varios grupos y tertulias artístico literarias de la capital vizcaína en los años cincuenta es considerado

exilio en parís y su afiliación al partido comunista aparece

y la palabra regresó a españa aunque la mayoría de su obra de los últimos años censurada murió en madrid en mil novecientos setenta y nueve por lo tanto se cumplía en marzo el centenario de su nacimiento la figura humana y literaria

aprovechando la efeméride del centenario de su nacimiento no

debería impulsar el propio gobierno un homenaje como ha hecho por cierto con otros escritores que escriben habitualmente

no se ha previsto por lo tanto ni realizar actos ni subvencionar o apoyar los que otras entidades o asociaciones hayan realizado o vayan a realizar con motivo del centenario esta es la realidad de los hechos nosotros pensamos que difundir la obra de blas de otero es apoyar la cultura

y la poesía y esto evidentemente es competencia de su departamento señora consejera se han organizado se han impulsado se han apoyado otros actos de homenaje para

lauaxeta iparraguirre nosotros lo que queremos es que se haga lo mismo

que decidieron escribir en castellano apoyamos por lo tanto que se apoye la celebración

de estos otros es un ejemplo en nuestra opinión del sectarismo y del nacionalismo excluyente de este gobierno que en el fondo no quiere que se lea

de la literatura en castellano esa es nuestra conclusión se han realizado o se van a realizar homenajes por parte del ayuntamiento de bilbao de ciudades como madrid

que quieren recordar a este poeta vasco y resulta que el gobierno vasco no impulsa ningún homenaje es un despropósito yo les pido que rectifiquen y que conmemoren el centenario del nacimiento del poeta blas de otero se lo merece el poeta

sabina de la cruz ekin bilboko olerkariaren lagun eta alarguna

hablando hablando hablando señor maneiro el respeto y admiración que este gobierno y yo personalmente

y la relación que este gobierno tiene con la fundación blas de otero es excelente

gure partetik ez da inolako oztoporik jarriko ordezkaritza maila hori argitzeko es cierto que el gobierno y tampoco ninguna otra institución no solamente el gobierno

no existe ningún mecanismo normativo que nos permita medir ese nivel de representación no existe tampoco ningún impedimento para plantearlo ante la nueva situación creada

en euskadi tal y como ha sido reconocido por el conjunto de los agentes sociales este nivel de interlocución puede variar conforme se reconozcan

algo que corresponde tanto a la representación empresarial como también a los propios sindicatos

egun on vamos a hablar de la pobreza laboral

euskadi cerró con seiscientos diecinueve personas desempleadas menos y también como dato curioso con cincuenta y dos perceptores más de la renta de garantía de ingresos es cierto que el dato del desempleo que el consejero celebró con moderación

es llamativo que el dato de la renta de garantía de ingresos no haya sido analizado ni por el consejero ni por el gobierno porque tiene una valoración muestra una tendencia al alza situándose en niveles similares a los del pasado verano el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos vuelve a estar en niveles

a cuando ustedes terminaron el estudio de la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia salarial el dato del desempleo tiene muchas lecturas

de estar apuntados en lanbide hay quienes han pasado del desempleo

y hay quienes acceden a empleos pero precarios de manera muy generalizada señor consejero no me negará que el dato del desempleo hay que analizarlo mirando también la evolución del número de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos hace un año mi grupo solicitó a su departamento información detallada de los colectivos demandantes de la renta de garantía de ingresos por edad y por situación laboral entonces los datos aportados

ha aumentado como demandante de la renta de garantía de ingresos es el de personas ocupadas o empleadas que a pesar de contar con un empleo cobran sueldos paupérrimos que son inferiores incluso a la renta de garantía de ingresos en el pleno monográfico sobre la estrategia integral

que se celebró en noviembre del dos mil catorce entre otras de las resoluciones aprobadas se instaba al gobierno a presentar en el plazo de seis meses a la cámara el estudio sobre la pobreza real precisamente derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia salaria

la intención no es otra que se puedan adoptar medidas dentro de nuestro ámbito competencial directas para corregir esa situación mandato que cobra relevancia frente a esta realidad que se está produciendo

ustedes cumplieron el mandato con notorio retraso y por presión de mi grupo parlamentario un año después el gobierno vasco remitió por fin a este parlamento un documento que ya en su momento le dije no enumera ni la definición de los conceptos ni la metodología utilizada y llama la atención que tampoco incorpore conclusiones en realidad no es un estudio es un informe que utiliza como única fuente

dentro de esa encuesta de necesidades del dos mil catorce recoge de alguna manera los datos que ustedes ya nos habían facilitado vía parlamentaria a través de preguntas escritas

hace un mes usted en esta cámara reconoció la existencia de pobreza laboral y el deterioro de las condiciones laborales expresó su preocupación pero eludió responsabilidad de su departamento y del gobierno ante esta nueva forma de pobreza que

para elaborar el nuevo estudio de pobreza y desigualdades lo que mi grupo hace hoy es una vez más en un asunto del que ustedes parecen no querer hablar ni abordar y no lo entiendo francamente señor consejero porque es lo que tenemos que hacer en este parlamento abordar y plantear qué vamos a hacer con esto porque ustedes allí donde comparan datos de desempleo al inicio y al final de su mandato evitan hablar de la realidad laboral

del emprendimiento que está ocultando realidades de autoempleo de autónomos y falsos autónomos sin derechos sin apoyos y sin coberturas

ocultan que muchos autónomos son trabajadores a los que despide una empresa y trabajadoras por supuesto y que se les recontrata como prestadores de un servicio sin derechos y con mucho menos salario y cuando se les recuerdan estas cosas ustedes ponen la preocupación y la queja y culpan al gobierno de madrid

es qué hacen o qué pretenden hacer ustedes y por eso viene esta interpelación lo que no sabemos es por qué por ejemplo no se incrementa la plantilla de inspectores de trabajo

esa competencia que tanto nos ha costado lograr y por qué no se hace un plan que detecte esas falsas contrataciones ese fraude contra los derechos de las y los trabajadores

taparlo con celebraciones diversas la pobreza laboral existe y ha venido a euskadi por desgracia para quedarse

energética que tanto les ha costado a ustedes reconocer y que nos costó mucho que entendieran que había que habilitar partidas para quienes no pueden pagar sus facturas de luz y gas y que no pueden acogerse a las ayudas de emergencia social

por situarnos recordaré que este concepto que está analizado por las autoridades europeas

la pobreza laboral es la combinación de quienes se consideran personas trabajadoras que son estadísticamente quienes hayan estado trabajando

ingresos inferiores al sesenta por ciento de la renta media eso es lo que sirve de referencia a las autoridades europeas pero para los socialistas es una medición que no refleja la realidad

una parte importante de personas afectadas por este tipo de pobreza es una manera de disimular la situación real del mercado de trabajo porque por ejemplo cuando hablamos de hogares como unidad

de medida de pobreza ocultamos la situación de la juventud que se convierte en dependiente sin posibilidad de poder independizarse

donde los ingresos totales superan el umbral de la pobreza definido no aparecen en los censos de pobreza laboral lo mismo pasa con buena parte de las personas que trabajan unos pocos

fuera de los estudios sobre pobreza en un contexto donde la flexibilidad laboral en muchas ocasiones obligada y desgraciadamente cada día más vestida de mujer es cada vez más frecuente no tener en cuenta estos colectivos y esto significa maquillar los datos por eso

se agarra su estudio ocultan una pobreza laboral que es mayor por no hablar que esta situación de dependencia como ya he apuntado se extiende a quienes pasan de ser trabajadores por cuenta ajena a falsos autónomos porque lo hemos dicho en unos cuantos debates si ustedes se están planteando esta cuestión y también lo expresó nuestra

la incidencia que tiene la pobreza laboral dentro del colectivo con empleos no estándar buena parte de las personas que acceden a este tipo de empleos lo hacen de manera forzada

y sobre todo las mujeres la obligación de tener que acceder a empleos de baja calidad las condena a la pobreza laboral y esta pobreza laboral además está situando a las personas en la exclusión laboral de forma más intensa

a los hogares monoparentales y a las que tienen menores a su cargo precisamente a quienes menos oportunidades tienen de origen ya sabemos que la culpa de la proliferación de este

es de la reforma laboral de rajoy pero en realidad también debemos atajarlo haciendo uso de nuestras competencias cubriendo las lagunas que se hayan creado porque en el pleno de ayer y hoy nos habrá oído en varios temas relatar como

recentralizadores esos ataques contra los vascos y las vascas que tantos titulares ofrecen tienen posibles respuestas y nosotros en euskadi tenemos forma de actuar

pero le puedo citar las competencias en políticas activas de empleo ya sé que no es un asunto del que le agrade especialmente hablar en este momento dado la que le está cayendo pero bueno entiendo que la incapacidad de su gobierno de ordenar las tareas de lanbide se ha hecho por desgracia evidente y es evidente y siento tener que recordárselo que aquello que el pnv en la oposición dijo que se arreglaba

de arreglar en cuatro años por eso ustedes tienen amplios márgenes para abordar esta cuestión

en este país dispuesto a abordar estrategias más osadas que contabilizar cada mes el número de personas desempleadas y el número de perceptoras de la renta de garantía lo que hoy nos interesa saber es si a pesar de que hay un mandato expreso desde noviembre del dos mil catorce que ha día de hoy no lo han cumplido

en marcha de esa estrategia vasca de lucha contra la pobreza laboral antes de que finalice la legislatura eskerrik asko sarasua

ematera nator dentro de las muchas paradojas que nos trae el mundo actual el momento económico y el mercado de empleo

ha garantizado la integración social hoy y ha sido su garantía ahora

pero no podemos negarlo está aquí ahora nos sorprendemos como se sorprende gran parte de los analistas del mundo del empleo

cuando observamos que no puede salirse de la pobreza a pesar de disponer de integración laboral podemos decir y debemos decir si no jugamos a un cortoplacismo politiquero ciego que quien tenga soluciones las aporte

porque mucho me temo que no es una realidad fácil de entender y menos de resolver

autor querido por muchos de nosotros y muchas ahora que sabíamos las respuestas nos han cambiado las preguntas horrela da nahi eta ez

y ulrich beck lo decía hace veinte años

argumento que sostenía diciendo que era más probable como estamos viendo desgraciadamente que las condiciones laborales de brasil se iban a exportar a europa y a contextos industrializados

que no se veía como verosímil que las garantías de las normativas laborales de europa

en este mundo de competitividad alocada de tecnologización radicalizada de automatización de procesos decaerá el empleo hoy acabo de dar los datos del último trimestre del pra en el interanual

afortunadamente y sin embargo veinticinco mil parados menos

qué diferencia qué diferencia si alguien tiene una varita mágica que por favor nos la enseñe estaríamos encantados de poder utilizarla

esta surización de nuestro norte este fenómeno que ha recibido hoy muchos otros nombres nos indican que no es nada fácil hacer frente a una situación que afecta especialmente como usted ha señalado señora sarasua a las generaciones más jóvenes a las mujeres con voluntad de emancipación

para una sociedad crecientemente envejecida como la nuestra

de alguna forma tenemos un presente difícil y un futuro incierto no lo voy a negar porque esto es la situación real aurreko

entonces decíamos y hoy seguimos diciendo que evidentemente tomamos medidas medidas de dos tipos por un

lo que estrictamente es pobreza laboral a través de distintos programas de activación laboral tanto de las personas que están en riesgo de exclusión como a través de toda la política de empleo y ciertamente las políticas de exclusión no son

como muchas otras cosas no lo son por lo menos en esto no fallamos

y de manera específica la inversión social con respecto a esta última a la inversión social sabe usted señora sarasua que el colectivo de personas ocupadas es uno de los que también se beneficia desgraciadamente del sistema de garantía de ingresos

por ello y en primer lugar hemos tenido que garantizar el mantenimiento o tenemos que garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema de protección social especialmente

defendiéndolo contra los ataques manifiestos que en los últimos tiempos también hemos sufrido defendiéndolo analizándolo

con respecto al colectivo de personas ocupadas que precisa de las prestaciones sociales disponemos de datos de las encuestas tanto de servicios sociales como de la de necesidades sociales que revelan que un tres coma dos por ciento de los hogares con personas ocupadas han accedido en algún momento durante los doce meses anteriores a alguna protección social desgraciado malo este acceso muestra una gran estabilidad con oscilaciones

de nuevo se puede comprobar en este caso las diferencias existentes

en el caso de hogares con alguna persona ocupada estable la proporción de hogares con acceso al sistema de protección social es del uno coma ocho en dos mil diez y dos mil catorce por debajo del dos coma tres

ahí estamos bien nunca estaremos bien hasta que no lleguemos al cero

segundo en el caso de hogares con población ocupada no estable el acceso al sistema de protección es muy superior un quince coma dos en dos mil catorce

del dos mil seis estamos mal tres

los hogares de población ocupada no estable se mantienen en cualquier caso como un segundo colectivo con mayor acceso relativo al sistema de protección

en cifras absolutas se ve sin embargo superado por la población en hogares de personas inactivas en dos mil catorce naturalmente de hecho un rasgo llamativo de la evolución reciente del acceso al sistema de prestaciones es la pérdida de importancia del conjunto de los hogares de población ocupada entre la población beneficiaria del sistema en dos mil catorce del grupo mayoritario en dos mil seis y dos mil diez

antes eran mayoritarios de todas formas

de muchas instituciones que miden o intentan medir la pobreza

los últimos años que esa no hace falta medirla porque la tocamos a veces las conclusiones de estos estudios se reflejan de manera parcial incluso interesada porque se mezclan situaciones de pobreza real

no es lo mismo utilizar un método que otro una medición que otra no es lo mismo estar en pobreza que estar en situación de riesgo con los datos que le he dado de acceso a la protección social es notorio es evidente que las situaciones de pobreza se han incrementado como consecuencia de la crisis no vamos a negar

no lo niego y no seré yo quien lo niegue nosotros manifestaremos que esto es una realidad contra la que tenemos que combatir tengo que decir que podremos hacer más que hemos hecho algo que hemos hecho bastante que incluso diré que hacemos lo que podemos

pero los signos de los tiempos a veces son los que son y el principio de realidad es el que es nosotros no podemos cambiar el mundo podemos

y en esto los signos son muy negativos

no sea como se nos presenta pero euskadi es demasiado pequeño como para que seamos capaces

el comportamiento global que nos afecta tan brutalmente sobre todo a los sectores más vulnerables eskerrik asko

estimado consejero me deja usted muy preocupada hoy le veo especialmente pesimista aparte de los datos

entiendo que estamos en el parlamento vasco y que ustedes son el gobierno vasco con sus competencias

y desde luego que yo si tuviera la varita mágica o mi grupo tuviéramos la varita mágica para acabar con la pobreza laboral desde luego ya la hubiéramos utilizado hace tiempo porque de eso se trata pero no es que este grupo parlamentario

usted no responde a la pregunta que le llevamos haciendo hace tiempo yo no le estoy diciendo

que dado lo que aquí se abordó en el pleno monográfico del dos mil catorce

si ustedes tienen pensamiento de elaborar una estrategia vasca de lucha contra esa pobreza laboral en el ámbito competencial que nosotros tenemos porque evidentemente

interesante porque he estado leyendo bastante últimamente sobre esta cuestión

y dice cosas muy interesantes habla de que la pobreza laboral hay que analizarla desde diversas definiciones y luego que hay que analizarla con las implicaciones que tiene en cuanto a la visibilidad de los colectivos trabajando y que no son

de vivir de su trabajo de manera independiente y de mantener a sus familias solo eso es importante y es verdad que no podemos cambiar el mundo pero tenemos que cambiar nuestro destino

futuras que son las que van a permitir mantener el estado de bienestar y construir el futuro de este país señor consejero y ahí hay que ser estrictamente ambicioso hay que diferenciar entre la pobreza laboral y los trabajadores y trabajadoras pobres cuyo empleo tiene un salario bajo y el análisis de la pobreza laboral debe hacerse de manera individual y complementándolo con la situación que hoy en día viven los hogares vascos

usted conocerá la memoria socioeconómica emitida por el ces en dos mil quince y bueno pues a ver creo que evidencia los efectos de la crisis en la comunidad autónoma vasca

da varias cositas unas son en negativo y otras son en positivo pero las negativas son mucho

mayores que las positivas dice apenas el cinco por ciento de los contratos suscritos tienen carácter indefinido aumentan los contratos temporales y la contratación parcial duplica las cifras anteriores a la crisis con una media de treinta y dos días por contrato señor consejero treinta y dos días por contrato

más bajos se incrementa el número de personas con desempleo de larga duración que han agotado sus prestaciones por desempleo otro factor negativo el desempleo entre los jóvenes menores de treinta años se ha quintuplicado desde el inicio de la crisis

otro factor negativo el gasto realizado en protección social

nos enfrentamos a una pérdida demográfica en términos absolutos agravada por la reducción del segmento de población

y por el progresivo aumento de los grupos de edad avanzada kontuz aumentan las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar constituyendo un freno a la natalidad

pero a costa de una mayor discapacidad y dependencia evidenciando la necesidad de políticas públicas que fomenten el envejecimiento activo que podría suponer un nicho de actividad económica y ahí sí puede estar el gobierno vasco en este escenario las políticas activas de empleo cobran aún mayor relevancia como elemento clave para el acceso al mercado de trabajo y el logro del bienestar social por eso su gobierno no puede ni debe visionar a lanbide como un organismo que gestiona únicamente prestaciones sociales este gobierno debe visionar a lanbide y le tienen que dar ustedes una vuelta

que tiene en este momento para ver a lanbide como un servicio de empleo público que ofrece orientación e intermediación laboral

para presentar esa estrategia vasca de lucha contra la pobreza laboral y analizar cuáles son las cosas que hay que cambiar desde este parlamento a futuro eskerrik asko

hacer una estrategia vasca de empleo tal y como la entiende este gobierno no va a ser posible hacerlo

principio de realidad lo cual no quiere decir que durante toda la legislatura este gobierno no haya tenido programas y planes que actúen contra la pobreza laboral no digo ni desdigo pueda ser y tenga que ser interesante unirlo en un plan estratégico pero quisiera seguir incidiendo en los datos y las medidas desde una posición más proactiva

no se centra solo en luchar contra la pobreza sino en facilitar estímulos al empleo y garantizar mayores niveles de bienestar a nuestra población

en segundo lugar tengo que decir que un aumento del número de beneficiarios de las prestaciones de rgi de

no significa un incremento de la pobreza laboral significa que estamos

en tercer lugar al mismo tiempo sin embargo es preciso tener en cuenta que la dinámica del sistema productivo en especial a través del incremento de trabajo a tiempo parcial

y demás prestaciones del sistema vasco de protección todos los datos que usted nos ha dado

son ciertos pero dónde hay menos desigualdad en el estado español

en cuarto lugar en periodos de vaivén como el que estamos viviendo es probable que las formas mas precarias en términos de contratación temporal y con baja remuneración aumenten traduciéndose en mayor demanda de acceso al sistema por parte

y en último lugar quinto hemos introducido mejoras en las ayudas de emergencia social aumentando su dotación presupuestaria también gracias precisamente a las enmiendas que ustedes introdujeron pero en cualquier caso cuando se refiere a lanbide le tengo que decir que esta semana

noticia por un aspecto de lanbide pero no ciertamente por el tema del combate a la pobreza laboral que es el que nos trae a cuestión aquí no ciertamente por eso

mejorable pero un buen recorrido en cuanto a las medidas laborales de largo recorrido

que garantice el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y la creación de nuevos puestos y como avancé ya en la comparecencia que hice en comisión realizada

creo que dimos una extensa información sobre nuestros planes sobre ochenta y nueve acciones que tratamos de poner en marcha que pusimos en marcha durante el dos mil catorce

puestos de empleo ayudar al mantenimiento de cincuenta mil puestos de empleo y mejorar la formación de ochenta y cinco mil personas de las cuales

los estudios que hemos realizados desde el gobierno nos indican que ciento veintisiete mil trescientos noventa y nueve personas se encuentran en situación de pobreza real

menos de la mitad o justo la mitad los datos de la encuesta de pobreza de dos mil dieciséis que vamos a presentar a finales de este año ayudaran a comprobar si las hipótesis que hoy he lanzado

a partir de ahí teníamos dos posibilidades rechazar públicamente ese proyecto de ley y quedarnos a la espera de su aprobación con los brazos o rechazar con contundencia el proyecto de ley y seguir peleando y como saben elegimos la segunda opción

ni porque pecáramos de ingenuos sino por responsabilidad era y es nuestro deber dialogar y hacer cuanto esté en nuestras manos para defender nuestro sistema educativo y nuestras competencias

en todas ellas hemos mostrado nuestro rechazo frontal a la ley mientras tanto hemos seguido trabajando por mejorar nuestro sistema educativo

minimizar el impacto de la lomce utilizando todas las vías posibles para ello

el programa de gobierno y los objetivos estratégicos establecidos en el marco europeo de educación y formación dos mil veinte el gobierno ha trabajado y sigue trabajando junto con la comunidad educativa

mediante propuestas dotadas de viabilidad y seguridad jurídica en este sentido he de subrayar que este gobierno no pondrá nunca en riesgo la trayectoria académica de nuestro alumnado

arrondo lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre

y sinceramente considero que tenía toda la razón lo que no se mide no se mejora por ello uno de los retos importantes para la mejora del sistema educativo

siempre en continuidad con las líneas desarrolladas hasta ahora consiste en impulsar un sistema propio de evaluación del alumnado que sea coherente con el modelo educativo pedagógico del plan heziberri dos mil veinte y es en eso en lo que estamos trabajando aunque ustedes se empeñan en torpedear nuestros esfuerzos escudándose en la lomce hemos dicho alto y claro en más de una ocasión que este gobierno está en contra de las reválidas

y no hacer ningún otro desarrollo normativo se lo volví a recordar hace tan solo dos semanas

ejecutando y esta sigue siendo nuestra postura esta misma semana más concretamente ayer estábamos convocados a una reunión técnica para la tramitación de los reales decretos de las reválidas

de educación que tenga el consenso mayoritario este gobierno celebra que esto sea así por supuesto pero mi pregunta es y ahora qué

o seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora en defensa de nuestros intereses es decir nuestros alumnos y alumnas siguen preparándose formándose y nosotros seguimos facilitándoles los instrumentos necesarios para una educación de calidad

derogada la lomce le aseguro que seré la primera en celebrarlo

de acuerdo con el marco del modelo educativo pedagógico del plan heziberri dos mil veinte
y de los decretos que lo desarrollan eskerrik asko uriarte andrea

la evaluación nunca se ha utilizada ni puede ser utilizada parea establece rankings complementariedad entre la evaluación interna y la externa

plantea la evaluación de todas y cada una de las competencias básicas a través de la valoración externa no se puede evaluar todas las competencias básicas

por tanto las propuestas de mejora por parte de los centros escolares se han de realizar teniendo en cuenta de forma complementaria los resultados de la evaluación externa e interna coherencia se trata de una evaluación totalmente coherente con el modelo educativo pedagógico es por tanto una evaluación por competencias y toma como referencia el perfil de salida

que conforman el modelo educativo pedagógico innovación y reto una de las características más destacadas de nuestro sistema educativo es su capacidad para avanzar sin rupturas y teniendo siempre en cuenta el largo y fructífero camino recorrido por el mismo la evaluación por competencias que propone

y por último pero no menos importante responsabilidad y cooperación el modelo de evaluación que plantea nuestro modelo educativo pedagógico es una tarea principal del equipo de profesores y profesoras pero también es una responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa profesorado alumnado familias y departamento de educación esta responsabilidad compartida conlleva la necesaria cooperación de todos los agentes implicados

consejeras consejeros señorías señora beltrán de heredia son muchas las ocasiones en las que los grupos y diferentes agentes sociales nos interesamos por las políticas que garantizan la libertad de las mujeres

una conciencia compartida y ampliamente sobre la necesidad de luchar de forma integral contra la violencia de género pero tenemos diferencias

fruto de estas preocupaciones permanentes el pasado dieciséis de marzo

y confirmó un dato que a los socialistas nos parece muy grave confirmó que las mujeres agredidas o que se sienten amenazadas y acuden a una comisaría fuera de los horarios establecidos se encuentran con la falta de unidades especializadas en violencia de género

y no me contestó por eso hoy le quiero volver a preguntar si las mujeres agredidas y amenazadas tienen

para buscar amparo y seguridad la violencia que

y puede ocurrir en cualquier momento día y hora por lo tanto señora consejera para salir de dudas dígame si todas las comisarías de nuestra comunidad cuenta con servicio especializado de atención a las víctimas

en todas las comisarías durante las veinticuatro horas los siete días de la semana gracias eskerrik asko

mire atendiendo a la exposición de motivos que hace en su pregunta tengo que decirle que me llamó la atención que el representante de

menciona de violencia machista en general que es de lo que habla lo que usted expone también

y a la atención horaria que prestamos a estos casos porque el matiz es importante verdad el concepto de violencia machista es amplio más amplio que el que abarca el servicio específico y repito servicio específico que la ertzaintza ofrece a los casos de violencia doméstica o de género

de la atención que se da a aquellos delitos cometidos contra las mujeres por sus parejas o exparejas y a las víctimas de violencia ejercida en el ámbito familiar o doméstico

continuas un servicio que está perfectamente definido soportado en métodos de evaluación elaborados por el instituto vasco de criminología de la universidad del país vasco y atendido por personal que ha recibido una formación especializada en el tema en estos momentos y a fecha dieciocho de abril la ertzaintza atiende cuatro mil seiscientos sesenta y uno expedientes que afectan a cinco mil doscientos noventa y seis personas el grado de satisfacción de las encuestas

víctimas es de una media superior de ocho coma cinco sobre diez no hay problema por tanto de atención a las víctimas no lo hay y mucho menos es un problema de horario de oficinas eskerrik asko

señora consejera no me ha contestado a lo que le he preguntado efectivamente yo le he preguntaba si en todas las comisarias de nuestra comunidad autónoma

hay unidades específicas para tratar los temas de violencia de género machista

con su gobierno desde el inicio venimos reivindicando sin que nos quieran atender que lo que hace falta es una ventanilla única una coordinación entre todas las instituciones locales forales y autonómicas para que una mujer agredida o amenazada no tenga que vagar para encontrar amparo

que no tengan que saber el horario de una comisaría que sepan que cualquier horario de cualquier día y en cualquier instancia va a encontrar el grado de protección que necesita en cada momento

contra las mujeres un problema de primer orden político y social debería atender esta reclamación y ustedes se empeñan en organizarlo de una manera

en comisarías a determinadas horas o como es la falta de unidades específicas en violencia de género es la política que vuelve usted mañana pero no es lo justo no es lo que necesitamos es una política que va dirigida a las víctimas

es un doble sufrimiento para ellas la agresión y la amenaza y la falta de amparo cuando se produce y ellas necesitan una respuesta más eficaz

y prioritaria no podemos permitir que las mujeres sufran una segunda victimización por alargamiento y complejidad de los trámites

investigar controlar al agresor esto hay que hacer y requiere tiempo requiere disposición de todas las horas del día de todos los días de la semana
un canal unificado de atención a las víctimas una necesidad gracias eskerrik asko fresno andrea beltrán de heredia andrea zurea da hitza

el servicio de violencia doméstica violencia de género es uno de los mejor valorados por las propias víctimas ha preguntado usted

de un servicio concreto no hay problemas de atención horaria nuestras comisarías son servicios de atención a la ciudadanía veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días al año

de los que tenemos conocimiento y muchas veces preventivamente incluso de oficio cuando hay riesgo de que esto se produzca y evidentemente actuamos siempre que tenemos conocimiento de los hechos delictivos pero cuando hablamos de este servicio que criticó

estamos hablando de algo muy concreto perfectamente definido y largamente trabajado

violencia de género que la ertzaintza ofrece a aquellas mujeres que han sufrido están sufriendo

que ofrecemos a quienes han sufrido o sufren violencia dentro del ámbito familiar o doméstico mira me remito una vez más a los datos a fecha dieciocho de abril

veintidos mujeres llevan pulsera protectora por orden judicial treinta y ocho van con escolta noventa y cuatro disponen de servicios de contravigilancia

saque usted misma las cuentas la violencia de género la violencia doméstica es un problema radical como usted ha dicho

integral ofrecemos comisaría por comisaría un servicio que está bien definido y correctamente atendido un servicio que se articula en función de los requerimientos que tienen esos expedientes que están abiertos y en función de las necesidades de protección y de prevención que requieren las víctimas

egun on consejera salgo a este estrado para preguntarle

forales donde se contemplaba la actuación de rehabilitación para el edificio

muchas han sido las preguntas que le hemos formulado desde el dos mil trece hasta la fecha sobre esta inversión no ejecutada y su respuestas se limitan única y exclusivamente a decir que está redactado el proyecto de esta actuación del edificio que alberga a la comisaría de la ertzaintza y al parque de bomberos desde enero de dos mil catorce con un presupuesto de ejecución

señora consejera ejecutar esta inversión es importante no solo porque resuelve los problemas estructurales que alberga en sí el edificio desde su construcción además y me remito a sus palabras de diciembre de dos mil trece estamos convencidos de que este proyecto de inversión tendrá un efecto positivo tanto en la economía

de ayala por eso le pregunto realmente cuál es el motivo de la falta de acuerdo entre el gobierno vasco y la diputación foral de álava respecto a esta actuación de rehabilitación del edificio

argumentación y me consta que su partido ha presentado una moción para debate en el próximo pleno del ayuntamiento de laudio el día veinticinco de este mismo mes y creo que a estas alturas no le voy a sorprender con informaciones que obren ya en su poder seguramente pero sí creo que

sus planteamientos de exigir al gobierno y a la diputación foral de araba una materialización urgente del proyecto exigencia obvia usted algún aspecto importante del por qué estamos en la situación actual en efecto la situación en la que se encuentra a día de hoy el proyecto de remodelación del edificio que alberga el speis

aquí en su exposición el edificio necesita un remodelado necesita afrontar un proceso de rehabilitación que solucione esos problemas estructurales y

euros dentro del marco general de ese acuerdo interinstitucional entre gobierno vasco y las diputaciones

económica el departamento de seguridad asumió el compromiso de redactar el proyecto de ejecución

redactado en enero de dos mil catorce y que se presentó en la diputación foral de álava donde su ejecución empezó a retrasarse sine die la diputación foral de álava en aquel momento

se entretuvo y nos entretuvo con exigencias radicales de modificación del proyecto original que poco o nada tenían que ver con el planteamiento estricto de la rehabilitación del edificio hoy por

estamos más cerca de empezar a abordar definitivamente

ajustándolo a las necesidades del servicio público de extinción de incendios y salvamento y a las necesidades de la ertzain etxea de laudio eskerrik asko

señora consejera está usted más informada que yo

es incomprensible que dos instituciones que firmaron aquel acuerdo en el dos mil trece

que pasados dos años y medio no se haya ejecutado esta inversión prevista precisamente como dicen ustedes para reactivar económicamente

señora consejera los acuerdos interinstitucionales son importantes pero más importante es cumplirlo y para ello hace falta voluntad

una vez más del desacuerdo queremos conocer la intención real de este gobierno respecto a la rehabilitación de un edificio que está enfermo en su estructura desde su construcción es obvio y evidente que exista una responsabilidad de su departamento

interinstitucional contempla única y exclusivamente la actuación

ustedes han querido aprovechar la oportunidad y hacer un dos por uno pero le recuerdo

más amplia y tiene más problemas que el parque de bomberos me consta que el problema radica precisamente ahí que el proyecto que ustedes han elaborado abarca la actuación envolvente de todo el edificio fachadas cubiertas grietas carpintería

que presenta serias dificultades en el acceso de los camiones al hangar en las salidas de emergencia en la zona de vestuario

los desagües se atascan la torre y el aljibe no se puede usar para las maniobras

por estar integrado en el edificio esto lo recoge una carta de los bomberos que enviaron a la diputación

que forman parte de la junta rectora del consorcio lo cierto es que a ustedes les corresponde la ejecución del proyecto y antes de licitar también les corresponde alcanzar un acuerdo con la diputación foral de álava no se ha dado entiendo que la responsabilidad también es de ustedes

señora sarasua rehabilitar el edificio ajustarlo a las necesidades de los servicios que ya alberga tiene sus exigencias

de seguir manteniendo sus actuales servicios sus necesidades funcionales y de espacio en ese

pero el cambio el hecho de redimensionar y reestructurar un servicio

hacerlo coincidir y ajustarlo al proceso de rehabilitación del edificio sí que puede generar nuevas necesidades funcionales y de espacio y esto es lo que la

ha evaluado ya nos consta que está en comunicación con el ayuntamiento de laudio y el proceso de definición del servicio público de extinción de incendios y salvamento

está ya muy avanzado por tanto como le he dicho antes hoy estamos más cerca estamos más cerca de empezar a abordar definitivamente la rehabilitación del edificio y así una vez abordado el proyecto el edificio seguirá albergando los servicios de seguridad que ya ofrecemos

de laudio desde la ertzain etxea y también aquellos servicios aquellos elementos

edificio seguirá siendo útil una vez realizada

el dinero sigue estando ahí para este objetivo eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako

para un recién nacido y es el mejor alimento también para los bebes que puedan tener necesidades especiales como son los niños inmaduros prematuros y de bajo peso los bebes alimentados con leche materna tienen una serie de beneficios ya que

células inmunitarias menor riesgo de padecer alergias reduce

reduce las infecciones gastrointestinales las respiratorias

por lo tanto es un factor de gran importancia para el desarrollo

tuvimos ya ocasión en esta legislatura o en la legislatura octavo de tener la comparecencia de la asociación de leche materna en euskadi en donde nos habló de los beneficios y

tal y como señala la misma organización mundial de la salud tenemos que decir que el parlamento vasco ya en dos ocasiones se ha pronunciado sobre esta ocasión el primer pronunciamiento fue en la legislatura

cuando el señor inclán estaba de consejero en concreto el

en el que se instaba al departamento de sanidad a que realizara en un plazo de tres meses un estudio sobre la creación de un banco de leche materna

las necesidades de los niños y niñas prematuros o de aquellos y aquellas con carencias nutricionales cuando hablamos de un banco de leche materna hablamos de un centro especializado responsable de la

de extracción procesamiento controles de calidad leche intermedia

posterior distribución bajo prescripción médica así como entrenar asesorar y capacitar recursos humanos desarrollar investigaciones científicas operaciones y prestar asesoramiento técnico

materna de leche humana concretamente y hay hospitales como el doce de octubre que han sido pioneros en implantar un banco de leche materna y otros hospitales también en valencia granada zaragoza mallorca extremadura y barcelona

un estudio en el que se analizaba en ese momento cómo estaba la situación

económicos población diana directrices para los bancos de leche y también

por los beneficios de la leche materna y obviamente se constataba que en euskadi no existía un banco de leche materna y las características que tenían que tener

el veintiséis de diciembre de dos mil trece en donde el parlamento vasco se ratificaba en el acuerdo

así como posibilitar la donación de leche en toda la comunidad autónoma además se le instaba al departamento de sanidad a promover la lactancia materna y también a instalar este banco de leche materna en ese caso concreto se estimó oportuno en el hospital de cruces nosotros desde el grupo popular

iniciativas siempre hemos mantenido una posición favorable a la instalación o a que el gobierno vasco también adoptara cuantas medidas y actuaciones fueran necesarias para la puesta en marcha de un servicio sanitario consistente en un banco de leche

hay que señalar también aquí que la propia asociación española de pediatría el año pasado en su congreso anual celebrado en bilbao reclamó la creación de una red autonómica

han sido incluso alguno de ellos por unanimidad y llegados a este punto señor consejero le queremos

a retrasar el cumplimiento de estos mandatos parlamentarios que como hemos señalado en mi intervención se han producido en legislaturas distintas y uno de ellos en esta

instalar definitivamente este servicio en la comunidad autónoma del país vasco besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

garrido anderea huelga decir que comparto plenamente con usted la consideración

y más cuando se trata de un recién nacido prematuro o con necesidades especiales se trata además de una recomendación tanto de la organización mundial de la salud

para la salud la nutrición y el desarrollo infantil proporciona todos los nutrientes

durante los primeros meses de vida sin que precise ingerir

bat gatoz horretan guztiz bat como digo y usted también ha señalado hay evidencias suficientes que demuestran que la alimentación con leche materna aporta muy importantes ventajas especialmente para los neonatos prematuros

dentro de ellos para los de muy bajo peso produciendo un riesgo significativo de complicaciones algunas han sido nombradas por usted

y en estos casos la leche materna de mujer donante puede ser una alternativa los principales receptores de leche materna donada a nuestro medio como se ha señalado son los bebes prematuros especialmente con peso inferior a mil quinientos gramos

inferior a treinta y dos semanas cuando sus madres no puedan proporcionar suficiente leche por las razones que sean como seguramente conocen también ustedes

euskadi dos mil trece dos mil veinte incluye entre sus líneas y acciones de forma específica le diré y leo textualmente promocionar proteger apoyar el mantenimiento y aumentar la duración de la lactancia materna por sus beneficios para la salud

como emocional además el decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil quince que publicó este gobierno el año pasado con la declaración sobre derechos y deberes de las personas en el sistema sanitario de euskadi recoge explícitamente en el artículo nueve el derecho de las mujeres a ser informadas y formadas en materia de lactancia materna con objeto de fomentar su utilización

y además recoge por primera vez y creo que no lo tiene recogido ninguna otra comunidad autónoma en el estado el derecho a amamantar a sus hijos e hijas

público porque no lo olvidemos la promoción de la lactancia materna lo fundamental es en el conjunto de bebes no solo en los prematuros de hecho la mayor parte de las políticas

van más en fomentar la lactancia materna y que no se abandone en los recién nacidos normales más que en los bebes prematuros hospitalizados berriz diot amagandiko

aldarrikapenean ere en cuanto al banco de leche como usted muy bien ha recordado en su interpelación

de esta cámara hace exactamente dos legislaturas el pronunciamiento decía y voy a leer textualmente el parlamento

a que realice un estudio sobre la creación de un banco de leche materna y como usted ha reconocido el estudio fue realizado y presentado en esta cámara que me ha entrado dudas si usted lo conocía

no apuntalaban precisamente la necesidad al menos una necesidad objetiva de un proyecto de ese calado en el estudio del dos mil ocho algo que supongo debieron tener en cuenta mis antecesores en la consejería

rafael bengoa cuando no decidieron poner un banco de leche materna

porque si no si la decisión hubiera sido otra hoy usted no me estaría interpelando también me ha llamado la atención que en la legislatura anterior usted no interpeló al gobierno con el cumplimiento del pronunciamiento del parlamento dos mil ocho

ni cuando dejaron de sustentarlo pero bueno debo reconocerle que soy consciente de que determinadas preocupaciones vienen y van en función de que se gobierne

pero coincido con usted en la importancia de la promoción de la lactancia materna no tenga usted ninguna duda también es llamativo que ni su grupo

ninguna enmienda en los presupuestos en este sentido ni en los de este año que ya estaba la proposición no de ley del año anterior ni en los de los años precedentes como ve

sencillamente no existe tal pretendido incumplimiento y desde luego se lo voy a reafirmar tenemos voluntad de cumplir con nuestro deber

y esto supone atender las proposiciones no de ley y las propuestas y aportaciones de esta cámara siempre que tengan el objetivo de mejorar la calidad del servicio sanitario que prestamos a las personas y que sean económicamente viables horretan gabiltza gauzak behar bezala egin behar dira

desde la dirección de planificación ordenación y evaluación sanitaria del departamento de salud y desde la dirección de asistencia sanitaria

se está trabajando desde hace unos meses en un análisis lo más exhaustivo y en profundidad

de las diferentes experiencias en bancos de leche materna de nuestro entorno geográfico tanto por el estado como en europa porque a usted no se la habrá escapado que los ejemplos que me ha puesto hoy desde esta tribuna

que afectaban únicamente a un hospital no me ha puesto usted ningún ejemplo de un banco de leche materna que cubra al conjunto de recién nacidos prematuros de una comunidad o de un país el estudio lo presentaremos en cuanto esté finalizado

demanda potencial de usuarios y de potenciales donantes para el banco de lecha materna situación cantidad y condiciones de los bancos de leche en el estado y en europa procedimientos relacionados con el funcionamiento de una estructura de este tipo y las diferentes

también incluye estimaciones del número de bebes prematuros que tenemos y también estimaciones del número de mujeres potencialmente donantes de leche materna y del número también de madres dispuestas a autorizar

porque tampoco son todas analiza también parámetros como la utilidad y la eficiencia y sobre todo hacemos mucho hincapié en la equidad

muy importantes en nuestra concepción de la salud para asegurar que no se generen desigualdades territoriales nosotros no vamos a optar

porque antes de tomar ninguna decisión de desplegar un proyecto de estas características estamos seguros que comparte con nosotros que debemos disponer de una base sólida sustentada en datos fiables

parte de mi primera intervención ha sido el estudio y obviamente

también tengo que recordarle que hay un pronunciamiento de hace

al gobierno vasco a instalar este banco de leche en euskadi en concreto en el hospital de cruces pero se le ponían deberes al gobierno y se ratificaba

y mire en las conclusiones de dicho estudio que hay que decir que es un estudio que tampoco es

de hojas y tampoco es muy prolijo en algunas

pues nos habla de los efectos de la leche materna que todos los conocemos

directrices de los bancos de la lecha materna y en las conclusiones desde luego

también nos habla de las características de los bancos de leche que podría tener una gran similitud con un banco de tejidos la existencia de un banco

muy positivos pero que efectivamente no ha existido un estudio serio sobre el volumen de leche a necesitar me imagino que en el estudio que ustedes están realizando que próximamente van a remitir a este parlamento

carencias que se vislumbran en este primer estudio que llevaron a que no se

pueda ser más concluyente y desde luego ese estudio como es de hace ocho años hace referencia a dos bancos de leche el banco de baleares y el banco

elaborando un estudio y que lo van a remitir a esta cámara

que se pronunciara en relación a la voluntad de este gobierno en relación a esta cuestión y más cuando su grupo ha apoyado estas iniciativas en esta cámara por lo tanto quiero decir que más allá de una posición de pose de mostrarse favorable a una iniciativa concreta queremos saber cuál es la voluntad real

sabiendo además que estamos al final de la legislatura pero mire

hay una sensibilidad ahora en relación a esta cuestión hay gente que obviamente no entiende

existir un servicio de estas características en euskadi y también hay personas

por eso más allá de que usted nos diga que nos va a traer un nuevo estudio que estaría muy bien que por cierto lo podrían haber hecho antes porque hay que decir que la iniciativa se aprobó en el dos mil trece

no creo que usted sea más torpe que el señor inclán por tanto ese estudio

haber adelantado mucho en esta cuestión y ya tener una opinión por lo menos del departamento
más clara en relación a si es favorable o no a la instalación de ese servicio en la comunidad autónoma de euskadi besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea erantzuteko

los calificativos de lento o rápido nunca son per se

se es más lento o se es más rápido comparado con

nosotros estamos tardando más en hacer el estudio que lo que se tardó en el año dos mil ocho ahora el problema no es

no tenemos ninguna duda de la importancia de la lactancia materna no tenemos ninguna duda de la promoción de la lactancia materna de hecho está incluido en el plan de salud que se hizo

y está incluido en el decreto de derechos y deberes de las personas en el sistema sanitario de euskadi por primera vez que está hecho el año pasado probablemente

el grado de beneficio que supone el coste de las medidas de promoción de la lactancia materna

de la promoción de leche materna para el número de prematuros que tenemos y yo no me voy a pronunciar hasta que no esté el estudio porque en cualquier caso si es viable se hará tal y como pidió el parlamento y si no es viable pues no lo que sí le adelanto es que la proposición no de ley planteaba un banco

no sé dónde puede estar ubicado pero en cualquier caso nosotros no queremos que sea para los niños prematuros

si tenemos que poner un banco de leche materna será para todos los recién nacidos

que creo que además es la interpretación lógica de la proposición no de ley que se aprobó le voy a dar algunos datos para que vaya usted sacando también conclusiones en el año dos mil quince el año pasado nacieron en euskadi

niños y niñas el setenta y uno por ciento recibió exclusivamente

una cifra francamente buena y de las mejores de cualquier país desarrollado donde siempre hay razones por las que no todos los niños

oscila en los últimos cinco años entre doscientos cinco y doscientos doce

al año si no cogiéramos solo los de bajo peso y cogiéramos todos los prematuros encontraríamos que con

recién nacidos que es la cifra correspondiente al año dos mil quince territorialmente treinta en araba sesenta en gipuzkoa y ciento ochenta y nueve

dado que el setenta y uno por ciento recibe lactancia materna de esos niños prematuros el setenta y uno por ciento

los lactará y también hay que partir de que también en ese porcentaje de niños

siempre va a haber un porcentaje de madres que opten por lactancia artificial antes de

o incluso antes de dar leche de otra mujer por lo tanto estamos hablando de una población diana usuaria del banco de leche materna en euskadi que oscilaría en el conjunto de euskadi entre sesenta y ochenta al año el tamaño influye hay cosas por las que es una gran ventaja que euskadi sea un país pequeño y hay otras donde no es tanta ventaja

de los recién nacidos en euskadi podrían ser clientes

materna insisto el estudio no está concluido y por tanto no tome como concluyentes las reflexiones que le estoy dando le estoy dando datos se hizo un estudio en dos mil ocho

que no fueron concluyentes a favor de dotarnos de un banco de leche materna yo en lo que conozco personalmente tanto al consejero inclán como al consejero bengoa

concluyente en este momento cualquiera de los dos en su periodo lo hubiera implementado por lo tanto esperemos a la conclusión del trabajo

si realmente hace falta o no y a la vez hay que responder dónde ubicarlo en qué emplazamiento para que si es que hay que ponerlo

gracias señora presidenta señor consejero la historia se repite la pregunta se repite por la inacción del gobierno vasco en la falta de adopción de medidas

mismos han reconocido lo reconoció usted en la comisión del veinte de octubre del dos mil cuatro y la voluntad de la dirección de osakidetza de la dirección del hospital también de solucionarlo

proveniente de dos infraestructuras hospitalarias en vitoria santiago y txagorritxu viendo no solo que los problemas persistían sino que

nosotros ya le formulamos una pregunta para respuesta oral en pleno el veinte de febrero de dos mil quince en donde le preguntábamos por los criterios que iba a adoptar para solucionar la situación y los problemas existentes en el servicio de digestivo por cierto problemas derivados de una mala planificación de una mala organización y problemas que claramente han repercutido en la calidad

entre los propios profesionales usted en esa respuesta nos decía que había una situación que mejorar y se quedó ahí pero posteriormente conocimos un informe

en donde se confirma claramente la existencia de una situación de conflicto manifiesto en el servicio de digestivo y que la situación de conflicto se remonta a noviembre de dos mil trece

como se deteriora el ambiente laboral con repercusión sobre los profesionales y se recomienda por parte de la dirección del centro la adopción de las medidas oportunas para la preservación de los derechos del conjunto de los profesionales dos años después señor consejero se puede decir que ustedes

dicho conflicto que se ha agravado y se ha enquistado por lo tanto estamos ante un problema que se ha agrandado por la inacción y la pasividad de su gobierno en este servicio con repercusiones concretas en la calidad de este servicio que se presta pero recientemente la sala de los social del tribunal superior de justicia en la comunidad autónoma

y polémica en el servicio y reitera otra vez que no se ha adoptado ninguna medida habla de que no se ha adoptado ninguna medida efectiva real y práctica para remediarla

ustedes tomado alguna medida preventiva cuando ya conocían ese conflicto en el dos mil trece

para la paliación del riesgo y se habla en concreto de los riesgos psicosociales aparte la concluye la sentencia con la reparación del daño ocasionado más una indemnización

obviamente será susceptible de recurso si ustedes deciden interponerlo lo han decidido

que claramente viene a decir que ustedes no han actuado en un conflicto que ustedes mismos
han reconocido y que esa inacción ha llevado a que se agravara el conflicto eskerrik asko garrido

habida cuenta que dispone usted de tanta información solicitación acaecida en el servicio digestivo

dispone de la asistencia a la que usted alude por lo tanto la habrá leído y habrá podido ver que es muy exhaustiva aparte de las dos frases que nos ha leído no voy a entretener yo a sus señorías leyéndoles muchas otras pero es muy exhaustiva y por supuesto

de que hubo una sentencia anterior que fue en primera instancia

sin discutir la sentencia del juez ha habido

ambos respetables por lo tanto no le voy a negar a usted que hay un conflicto conflicto

que no generado en aquellos sitios donde trabajan y coinciden personas

faltaría más mire usted en su propia casa pero bueno contestándole de manera directa qué vamos a hacer nosotros con la valoración de la sentencia pues mire

respeto total a las decisiones judiciales seguiremos trabajando con las personas eskerrik asko darpón jauna

mire señor consejero tengo poco tiempo pero como representante pública que soy de los ciudadanos

no solo por las personas afectadas sino por personas usuarias del servicio que me han constatado

de adopción de medidas por parte de su departamento que es lo que le viene a decir la sentencia no me hable de la otra sentencia que aborda otra cuestión esta sentencia dice claramente porque cuando hay relaciones humanas puede haber discrepancias pero aquí estamos hablando de conflicto dice claramente que ustedes no han hecho nada

garrido anderea a usted le gustaría que yo estuviera en la luna pero no yo estoy en el hua estoy

estoy en los centros de salud y hablo y conozco mucho más a los profesionales sanitarios que a los que usted llega si tiene alguna queja

de usuarios que es verdadera nuestra preocupación para los que trabajamos todos

y sin conflicto mire como se puede imaginar porque ya lo ha dicho vamos a respetar el fallo judicial pero por supuesto también en el ejercicio de nuestras competencias y de nuestra responsabilidad vamos a utilizar los mecanismos judiciales existentes por lo tanto habida cuenta que contra dicha sentencia cabe recurso de casación

interponerlo el motivo de esta decisión es que la sentencia de primera instancia

de la recurrente dicha desestimación tal y como se cita

recogió sesenta y tres argumentos que sirvieron de base a la primera desestimación

queda acreditado y así lo reconoce el juez que no ha habido ninguna actividad de acoso a la demandante y dice además textualmente

no existen jerarquías sino primos inter pares y con todo el respeto a los fallos judiciales

hay jerarquías hay gerencias hay direcciones hay jefaturas de servicios hay supervisiones de enfermería y para que no quede duda le vuelvo a reiterar que respetamos escrupulosamente el fallo

he vivido con responsabilidad en gestión de la integración

es francamente difícil integrar servicios distintos con personas distintas con jefaturas distintas a veces con culturas distintas

que a veces han competido entre ellos y somos organizaciones muy grandes lamentamos profundamente

sí buenos días buenas tardes señora consejera señorías

hemos aprobado iniciativas generalmente por unanimidad instando al gobierno a que ejecute aquellos acuerdos que tiene comprometidos para realizar las obras de infraestructura hidráulicas en álava a día de hoy

alcanzado casi un veinticinco por ciento se ha hecho el resto esta pendiente y nuestra pregunta es si es criterio del gobierno
ejecutar las obras pendientes eskerrik asko

con respecto a la pregunta que me formula relativa a las obras pendientes en materia de abastecimiento y saneamiento en el territorio histórico de araba le voy a dar dos datos importantes por una parte el compromiso adquirido por este gobierno en el acuerdo marco que se suscribió con la diputación foral de araba en el año dos mil ocho fue del cincuenta por ciento

pues bien en este territorio solamente en materia de abastecimiento y saneamiento este gobierno en el periodo dos mil ocho dos mil dieciséis

seiscientos setenta y siete euros por lo que prácticamente duplica la cantidad a la que se comprometió si a esto le añadimos lo que se ha invertido en materia de mantenimiento conservación mejora ambiental restauración de masas de agua

programas de seguimiento y estudios de masas de agua vertidos aforos planes el importe invertido en ese periodo en el territorio de araba por el gobierno vasco asciende

euros una cifra nada desdeñable que corrobora sin lugar a dudas el compromiso de esta administración en aras a una mejora inequívoca del estado ecológico de las masas de agua
y de los servicios de abastecimiento y saneamiento eskerrik asko eskerrik asko oregi anderea

obligación diría yo que ejecuten aquellas infraestructuras de abastecimiento de saneamiento y depuración

de las obras pendientes de los acuerdos marco no de otras cosas que ustedes van incorporando para justificar lo que no han hecho por lo tanto si vamos

de las obras del acuerdo marco le repito no sé si me entiende pues en ese contexto de responsabilidad se firmaron los acuerdos y francamente viene toda la legislatura improvisando respuestas ahora ha tocado esa pero usted vive en la improvisación

mes y medio lo que han dicho ustedes digo usted como consejera

álava que formaba parte de su gabinete hasta hace un año y decía el señor diputado de álava que

la depuradora actual y si el estudio es favorable ura ejecutará la misma en base al acuerdo mar usted en esta cámara a los diez días nos dijo que bueno señorías las obras se están recogidas en los planes hidrológicos

y tenemos plazo hasta el dos mil veintisiete pero es que luego vino el director de ura a las juntas generales de álava y preguntado por las infraestructuras

para los que no tenemos dinero para la gasolina para el mantenimiento o para pagarlos eso dijo su director

para álava un lujo que no nos lo podemos permitir porque no lo podemos costear

vamos a hacer una reflexión sobre un modelo de gestión una reflexión que la tienen que hacer los ayuntamientos la diputación y el gobierno

si ustedes van a ejecutar las obras porque llevamos cuatro años diciendo que sí lo van a hacer y acaba la legislatura y lo que nos ofrecen es un periodo de reflexión reflexión que viene del dos mil cuatro que se firmó el primer acuerdo que llevamos doce años

pasiva que esas obras están en el plan hidrológico y que ustedes no las van a hacer

de otras cosas yo le hablo de lo pendiente lo que usted ha dicho que está dentro del plan hidrológico

y que así lo dijo su director mire toda una legislatura mintiendo mareando la perdiz toda una legislatura divagando

sin hacer nada en álava de los compromisos adquiridos nada absolutamente nada tenemos

mire señora lópez de ocariz la realidad es muy tozuda y hemos invertido mucho

en la primera parte de esta intervención pero no quiere decir eso y no es menos cierto que todavía hacen falta infraestructuras importantes para mejorar los sistemas actuales de abastecimiento y saneamiento

y eficiente y es por ello que apelamos no sé si con las palabras más afortunadas en algún momento

y mi equipo a que especialmente en el territorio de araba

de gestión y gobernanza de dicho sistema en colaboración con los entes locales que son los responsables del mantenimiento y la explotación como usted sabe las infraestructuras en materia de abastecimiento y saneamiento son muy costosas para implantar pero no menos costosas para mantener y explotar de una manera correcta

como no puede ser de otra manera estamos junto con la diputación foral de araba definiendo la priorización de dichas actuaciones recogidas como le expliqué también en otra ocasión en el plan hidrológico

parte también la atlántica que deben ser acometidas para que entre las administraciones podamos implantarlas cuanto antes

era un acuerdo marco que luego debía de ir seguido de acuerdos de convenios concretos con financiación concreta en función

determinados cuáles eran las soluciones técnicas y siempre supeditado a la disponibilidad presupuestaria y como tal se van adaptando las inversiones

y por poner solo un ejemplo el estado español tiene comprometidas con araba desde hace muchos años

con los colectores y dos sedares la presa de herrerías o erbi en una u otra alternativa un embalse en korrosparri

ninguna noticia tampoco se cumplen estos acuerdos eskerrik asko eskerrik asko

le formulo una pregunta ante el pleno para que con sus palabras en sede parlamentaria los vecinos

entre otros puedan quedarse más tranquilos y sepan que sus problemas derivados del metro de

por su barrio van a tener solución acabando con la pesadilla que supone padecer constantemente ruidos vibraciones y grietas en sus viviendas

y darles seguridad para que sepan que este verano van a poder estar

los vecinos de san ignacio ya hace meses que emprendieron una auténtica cruzada ciudadana

que consideraron al ayuntamiento hasta al parlamento europeo creo

y a su gobierno los vecinos de san ignacio confían en que esta vez sí que esta vez a la tercera va la vencida porque desde hace ya dos décadas que se inauguró el metro

no es la primera vez que se movilizan para quejarse de los problemas que tienen

en san ignacio recuerdan que sus problemas empezaron ya desde el inicio y que en aquel entonces ya tuvieron grietas en fachadas

se comprometiera a solucionar de forma definitiva esos

pero hoy piensan que sus acuerdos se cerraron en falso ya que en el presente se han vuelto a ver obligados a movilizarse

los vecinos volvieron a la carga recabando firmas para volver a exigir a las instituciones que resolvieron los problemas provocados en sus casas por el metro señora oregi para que estos vecinos para estos de bilbao ya llueve sobre mojado están cansados se les va minando la moral y es lógico que recelen

solucionarlo del todo por eso le pregunto qué ha hecho su gobierno para solucionar los problemas de los vecinos de

provocados por las vibraciones del metro a su paso por este barrio gracias eskerrik asko

buenos días señora ruiz efectivamente conocemos la problemática relacionada con la vibraciones del metro en metro bilbao a la altura de san ignacio a través

que dicho sea de paso evidentemente nos ha tenido a todos sus miembros perfectamente informados de esta cuestión

concretamente el desvío que dirige alternativamente los trenes a la línea uno y dos este desvío

más de mil cada día y sufre un desgaste notable

han estado analizando este problema de una manera muy pormenorizada y finalmente han optado por la sustitución del aparato de vía

que debería de resolver los problemas de vibraciones detectados los trabajos de sustitución y mejora del nuevo aparato de vía y fijaciones se está llevando a cabo

los trabajos comenzaron en semana santa y tienen prevista su finalización en junio eskerrik asko eskerrik asko oregi

las explicaciones me consta que técnicamente tiene su complicación de hecho

lo que me preocupa es el escepticismo que siguen teniendo los vecinos a pesar de que ya están en marcha las obras porque el colectivo de afectados no descarta parece que mantiene su determinación de llevar a los tribunales a metro bilbao

por qué ese empecinamiento si se están poniendo manos a la obra

qué es lo que les hace tener dudas o de que estas obras que se van a acometer no van a ser

que son medidas demasiado sencillas para la gravedad de las deficiencias que padecen quizá usted lo pueda también aclarar cuando hablas con ellos lo cierto es que te cuentan testimonios que es que son inadmisibles cenando en casa y que se te mueva la vajilla cada tres minutos en hora punta

paciencia del más templado son fisuras en cimientos es decir que la naturaleza ya
de los inconvenientes que tienen son suficientemente graves como para que se queden tranquilos definitivamente gracias eskerrik asko ruiz andrea oregi andrea zurea da hitza

problema complejo y solución compleja también están como decía antes han estado estudiando los técnicos de consorcio y de metro bilbao de una manera muy pormenorizada y la solución y que está ya llevándose a cabo como decía comenzando en esta semana santa y con la finalización prevista en junio pues confiamos en que sean suficientes y así lo estiman los técnicos para resolver los problemas que se han detectado es cierto

puede haber desconfianza por parte de los vecinos o de los que están sufriendo las consecuencias porque cuando las molestias son importantes y como usted bien ha

muchas veces es difícil luego vencer las desconfianzas a que eso ya se va a arreglar en cualquier caso nos están pidiendo tanto usted como los vecinos nos están pidiendo

y yo les pido que tenemos que confiar en los técnicos y las técnicas de metro bilbao y consorcio de transportes en este caso confianza en su capacidad y su solvencia

para hacerlo bien y para hacer lo que se necesita después de haber hecho los análisis y después de haber propuesto soluciones para nosotros la garantía son ellos en cualquier caso

monitorizar esa implantación y que las consecuencias efectivamente los resultados sean los que se han esperado en el diseño de esta solución eskerrik asko

que se proponían en su día de proteger del parque natural de los montes de vitoria que lo proponía el ayuntamiento de vitoria

protegiendo como zona de especial conservación que nada tienen que ver además con la zona afectada ahora por el tramo de la línea de alta velocidad burgos vitoria

de montes de vitoria sí que estaría como parque natural y tendríamos otra figura de protección para proteger ante un proyecto que es devastador con el medio ambiente y habría que hacer una evaluación de impacto ambiental sobre ese proyecto que hoy en día no hay que hacer porque usted no ha querido que los montes de vitoria sea parque natural y lo sabemos por qué no lo ha hecho porque ustedes sabían hace tiempo

porque sabían ustedes hace tiempo que ahí el gobierno vasco tenía pensado hacer dos sondeos de fracking

y por eso ustedes una vez más han priorizado los intereses económicos de unas empresas ya sean constructoras o energéticas por encima del medio ambiente una vez más la consejera del medio ambiente del gobierno vasco ante un choque entre grandes infraestructuras ya sean energéticas o en este caso ferroviarias o el medio ambiente vuelve a dejar

dejando otros intereses por encima del medio ambiente por qué no han protegido los montes de vitoria han hecho alguna alegación
a la línea de alta velocidad burgos vitoria eskerrik asko maeztu jauna amaitu da denbora

señor maeztu no sé si conoce usted la definición de desarrollo sostenible yo sí

y la concertación que es necesaria para trabajar en el territorio yo sí

el parque natural propuesto marcaba unas hectáreas como las que usted ha dicho trece mil y pico definía unos ámbitos y se había hecho

en ese territorio en el plazo de alegaciones todas las juntas administrativas o prácticamente todas no tengo aquí el dato concreto

que les sacásemos de la delimitación

prácticamente todos los suelos agrícolas entre los montes

hemos debatido mucho sobre ese asunto en esta cámara aquí en la comisión

usted lo vuelve a traer ahora por el tren de alta velocidad

desde el dieciséis de diciembre del año dos mil quince por supuesto que hicimos alegaciones

no ha tenido que terminarse los dos meses que estuvo expuesto al público para que nos enteráramos y tres meses o cuatro meses después venir aquí a pedir cuentas a los demás por supuesto que hicimos alegaciones hicimos alegaciones tendentes a proteger los valores de los montes de vitoria

y esperamos y velaremos porque sean tenidas en cuenta dentro de la redacción del proyecto que seguirá a ese estudio informativo pero el tren de alta velocidad va a pasar y lo que tenemos que conseguir es que pase de la mejor manera posible y conservando
nuestros valores naturales culturales y territoriales eskerrik asko oregi anderea gai zerrenda agortu denez